agortu ez dela uste dugu a pesar de este avance

en pie de igualdad respecto a sus competidoras en el entorno europeo creemos que la factura eléctrica sigue necesitando cambios importantes además y una limpieza a fondo para alcanzar un modelo energético diferente que nos equipare a países como francia o alemania creemos que esta cuestión

por lo tanto le pregunto qué opina usted en torno a esta cuestión y qué planes tiene su departamento si los tiene para hacer frente a este reto que le planteo aldez aurretik eskerrik asko

desagertzea eta berriz esan behar da diskriminazioa desagertzea es decir existía una incorrecta asignación de lo que eran los peajes que sufrían nuestras empresas una incorrecta asignación que hacía que nuestras empresas tuvieran una situación de discriminación frente de su entorno más próximo y lo que se ha conseguido es efectivamente en dos etapas el conseguir llegar a una situación paritaria el evitar esa discriminación

hacer desaparecer esa discriminación se ha hecho en dos fases lo comentábamos y supone desde luego que se encuentren en una situación competitiva similar hay que señalar que además en dos mil trece empezamos a trabajar ese tema como consecuencia de que los cambios estructurales que se habían introducido

todavía peor luego la situación actual ha permitido que se rebaje y se iguale esa situación y la rebaja es de un cuarenta y tres por ciento estaba cifrada en cien millónes de euros lo que nuestras empresas pagaban por tanto es una buena noticia sin embargo como usted decía no es la única puesto que en ese dos mil trece ante los cambios estructurales el gobierno vasco se reunió con las empresas

y adoptamos un acuerdo de establecer una serie de actuaciones y de hacer una solicitud de medidas que permitieran igualar la competitividad

que se encuentran en un entorno cercano europeo ya nos podemos considerar todos como que estamos en un ámbito prácticamente único en todo el entorno europeo y que

plantas en euskadi y plantas en francia en alemania en italia en otros lugares se encontraban con que las plantas funcionaban realmente distinto existen otras medidas para

y se las hemos planteado en más de una ocasión al ministerio medidas que van muy asociadas a lo que es la desaparición de ciertos impuestos que no deberían estar en esa factura que estamos abonando las asociadas a la interrumpibilidad y otras tantas medidas que desde luego vamos a continuar trabajando y

como con la de transición energética vamos a tratar de implementar y que nos permitan desde luego establecer una tarifa energética

que se utilice la energía también como factor de competitividad es un elemento que creemos crucial

de estas próximas semanas vamos a continuar trabajando eskerrik asko eskerrik asko

el suyo renuncie al adoctrinamiento en las aulas

fuerza de este país y eso supone gobernar de espaldas a la mayoría de la ciudadanía y en este caso de espaldas a un gran sector que es el de la educación usted ha decidido hacer

un proyecto político salvaguardado por el estado español que limita nuestras competencias que no cumple la ley dinamita las decisiones de este parlamento y amputa nuestros derechos balioan jarri nahi dut legebiltzar honetan

nuestro objetivo señora iriarte es trasladar al parlamento el consenso ya alcanzado con el mundo educativo más del setenta por ciento de acuerdo en el consejo escolar de euskadi

sumar más acuerdos entorno a la educación lograr aquí el consenso logrado con las personas expertas y el consejo escolar incluidas todas las redes esta es la prioridad eskerrik asko

a cambiar en las políticas de su gobierno para conseguir apoyos a los presupuestos eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor martínez hace seis semanas dos de octubre el departamento de hacienda y economía presentó el marco presupuestario

esa reunión prueba nuestra disposición a incorporar cambios porque se organizó de forma previa al consejo de finanzas y a la aprobación del proyecto de presupuestos y usted señor martínez conoce personalmente nuestra disposición a recibir propuestas

respetando una negociación no extrapresupuestaria una negociación con realismo y una negociación sin hipotecas de futuro tres principios planteados desde el primer día con absoluta claridad a partir de ahí todo está por hacer eskerrik asko

uno venden ustedes que aumenta el presupuesto para igualdad entre mujeres y hombres la realidad es otra

porque la verdad es que lo que hacen es inflar el presupuesto con unas ayudas que según ustedes mismos son literalmente perversas al cronificar la brecha salarial o bien inflan con otras ayudas a la conciliación para las que no hay

ni se le espera según la señora artolazabal hasta finales de dos mil diecinueve dos cuando empiezan a asomar los nubarrones de la desaceleración económica este presupuesto lejos de tratar de anticiparse y cuidar el empleo

solo va a servir para tapar las pérdidas millónarias de verdaderos agujeros negros de la administración vasca como son

de la naval en cambio no quieren ni oír hablar y para las comarcas en crisis solo

tres juventud planes y planes los mismos de siempre los mismos que según las liquidaciones presupuestarias del año pasado

gastaron cero euros en dos mil dieciocho exactamente igual

van por el mismo camino la realidad

permítame que le diga algo por extraño que parezca

de sus altos cargos sea gasto social igual que no están esforzándose mucho a fondo buscando acuerdos con nadie para sacar adelante los presupuestos

que ustedes no están por la labor de cambiar ninguna de sus políticas ni las de su gobierno

día sí y día también de manera continua pero le digo más no solo buscan la prórroga casi parecen que también buscan un chivo expiatorio al que echar la culpa de la prórroga

gracias señor martínez porque ha dicho que iba pasando el tiempo y ha terminado diciendo que aún queda tiempo eskerrik asko

usted sabe que estamos trabajando sobre la base del documento que presentaron al departamento y usted sabe que la capacidad adicional de gasto es de trescientos setenta millónes

por atender el incremento retributivo de la función pública o por los acuerdos de educación o por la carrera profesional de osakidetza objetivos que creo que ustedes comparten

en positivo de nuestro proyecto el proyecto de dos mil diecinueve señor martínez avance en el capítulo de personal que crece

en inversión propia que crece un siete coma cuatro por ciento en innovación un seis coma cinco por ciento avance en educación que crece un cuatro coma cinco por ciento

el setenta y siete coma nueve por ciento del presupuesto este es un presupuesto social señor martínez es el presupuesto más social que usted conoce y usted lo sabe el presupuesto se puede discutir y cambiar por supuesto pero haciéndose cargo de la realidad y solo le pido la misma vara de medir

con los presupuestos generares del estado le pido que den aquí

que han dado allí asumiendo los objetivos de déficit y deuda

la inversión y los compromisos en las políticas públicas ustedes saben que este país crece que crea empleo

por supuesto que podemos mejorar de hecho este presupuesto es mejor que el anterior ahora bien

supone hacer perder una oportunidad a toda la sociedad disponemos de recursos para incrementar el gasto público las políticas sociales y la inversión

de crear más y mejor empleo de garantizar mejores servicios públicos y atender a quien más lo necesita mire señor martínez si ustedes aplican los criterios de rigor presupuestario y prioridad social que han asumido en madrid el acuerdo aquí señor martínez el gobierno sigue abierto al acuerdo y usted lo sabe se lo reitero aurrekontuaren inguruko akordioa

señora consejera me ha podido escuchar desde esta tribuna manifestar que la violencia

que constituye una violación grave de los derechos humanos sé que coincido con usted en la opinión de que la violencia que se ejerce contra las mujeres es una de las lacras más insoportables que tiene nuestra sociedad una violencia

en los diferentes ámbitos de su vida es por ello que defendemos que la violencia de género hay que abordarla desde políticas de igualdad plena porque solo desde esta igualdad plena

sin limitaciones impuestas por estereotipos de género nos queda mucho camino por recorrer porque siguen existiendo comportamientos machistas firmemente arraigados

y existen otro tipo de actitudes que en principio pueden parecer banales sobre todo si se practican por personas jóvenes pero que pueden llegar a convertirse en actos claramente violentos

a las medidas de reinserción para las personas que hayan tenido relación con la ley penal ya en mil novecientos noventa se creó el servicio de asistencia a la reinserción

un servicio que se consolidó de la mano de los convenios firmados en dos mil once entre el ministerio de interior y el gobierno del lehendakari patxi lópez siendo entonces consejera de justicia y administración pública idoia mendia estos convenios

que gestiona las medidas alternativas a la prisión uno de los programas que destacan dentro de este servicio vasco de gestión de penas por su metodología por la metodología que emplean y por los resultados que ofrecen es el denominado programa gakoa dirigido a la reeducación

el objetivo del programa gakoa no es otro que preservar la integridad física y psíquica de mujeres víctimas de violencia de género una iniciativa que aborda un fenómeno que es complejo

que debe de recibir exclusivamente la repulsa y la condena sin embargo pienso que todos los esfuerzos que desde la administración se hagan para la rehabilitación y reinserción de los victimarios deben de ser aceptados y valorados el programa gakoa lleva implantado lo sabemos desde hace diez años la referencia si contamos de este programa desde las memorias del servicio vasco de gestión de penas y desde los informes del tribunal superior de justicia son

y yo sé que ustedes desde su departamento han querido constatar y ratificar estos datos para ello han encargado al instituto vasco de criminología la elaboración de una evaluación

en unas jornadas abiertas la próxima semana unas jornadas en las que además se va a ofrecer un amplio debate y ponencia sobre la violencia de género y sobre las medidas de prevención

consejera quisiera que hoy a este pleno nos adelantara el balance que su departamento hace de este programa gakoa muchísimas gracias eskerrik asko

señora castelo creo que todos y todas coincidimos con usted en la gravedad que supone para nuestra sociedad la violencia contra la mujer también coincidimos en que la mejor manera de acabar con estos comportamientos violentos y antisociales es la rehabilitación y reeducación

ponemos en el centro de nuestra actuación a la víctima su seguridad e integridad para ello contamos con diversos servicios y programas dirigidos a las víctimas pero también desde la perspectiva de la víctima es importante que tratemos al victimario tratando que este corrija su actitud

y modifique y erradique su comportamiento para acabar con este tipo de violencia es preciso educar y prevenir

y evitar la reincidencia el programa gakoa tiene esa misión lleva funcionando más de diez años y desde dos mil catorce forma parte del servicio vasco de gestión de penas como ha señalado la señora castelo el colectivo al que va dirigido es muy concreto se trata de

delitos de violencia contra la mujer a menos de dos años y que no tienen antecedentes personas a las que un juzgado les suspende la pena mediante un informe favorable

con el programa individualizado establecido este plan se aplica entre año y medio y dos años el objetivo es el cambio actitudinal y de comportamiento ante las mujeres y pretende prevenir la comisión de futuros delitos es decir que no haya nuevas víctimas

superen sus taras iniciales se integren en planes formativos en igualdad de género y acaben actuando como agentes para modificar las actitudes machistas

de su entorno como usted señora castelo ha dicho hemos encargado una evaluación externa del programa con el fin de conocer científicamente el alcance de los resultados sobre todo en lo que respecta a la reincidencia en los hombres que han completado

con mucho gusto voy adelantarle algunos datos muy significativos de la evaluación que confirman la positiva impresión que sobre gakoa teníamos y que compartíamos con otras instancias la evaluación elaborada por gemma barona idoia igartua y auxkin galarraga del instituto vasco de criminología

divididos en dos periodos entre dos mil seis y dos mil diez se analizaron ciento cuarenta y ocho expedientes resultando un porcentaje de nuevas denuncias por violencia de género

en el periodo dos mil once dos mil dieciséis se analizaron doscientos setenta y ocho expedientes con una tasa de reincidencia del ocho coma veintisiete por ciento por cuestión

pero creo que el simple hecho de esta evolución positiva de la no reincidencia es un dato que nos permite adoptar una actitud optimista respecto al programa gakoa

intercambiar buenas prácticas y posibilitar el debate sobre esta realidad hemos organizado los próximos

unas jornadas en las que presentaremos este programa y la evaluación de su intervención en las que contaremos también

y otros profesionales que tienen relación en la intervención con victimarios estoy segura de que serán un éxito lo mismo que el programa en cuestión eskerrik asko eskerrik asko

la unidad didáctica herenegun que es una unidad didáctica diseñada

la historia reciente de euskadi de violencia y en teoría también del terrorismo de eta

ha despertado críticas en grupos parlamentarios al menos en dos incluso entre su socio de gobierno

de esa unidad didáctica con motivo de este rechazo de este revuelo

esa preocupación serena y objetiva razonable también que ha despertado usted ha manifestado públicamente su voluntad de cambiarlo o está abierto a su modificación queremos preguntarle qué está dispuesto a cambiar
de la unidad didáctica herenegun señor lehendakari eskerrik asko sémper jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor sémper estamos en fase de aportaciones

lo que estoy dispuesto a cambiar hasta conocer todas las aportaciones y mi valoración es que tenemos todos todos mucho que mejorar

y hacerlo con mayor discreción sin estridencias tenemos voluntad tenemos foros y tenemos tiempo para lograrlo en qué se puede mejorar

y solo hay dos límites uno en el proyecto presentado

del terrorismo de eta ni cualquier otra violencia y dos no se puede omitir ni ocultar ningún hecho que en estos sesenta años haya supuesto un ataque grave a los derechos humanos y al derecho a la vida a partir de esas premisas está construido el proyecto de unidad didáctica

lo que sucede señor lehendakari es que para acercar posturas como usted pide no podemos renunciar a la verdad

entre nosotros no nos puede pedir que renunciemos a lo que es objetivo

mire en ese documento en esa unidad didáctica singularmente la parte audiovisual se da bola a eta se justifica a eta hay testimonios que aparecen en esa unidad didáctica que insisto y esto es muy relevante van destinados a chicos entre quince y dieciocho años que no han tenido la experiencia vital personal

que van a recibir en sus escuelas en sus ikastolas en sus colegios

falsa mentirosa y complaciente con el terrorismo mire en esa unidad didáctica no hay un solo testimonio que justifique o relativice el franquismo como es natural no hay un solo testimonio que justifique o relativice el terrorismo del gal como es natural

como es natural hay testimonios que justifican el terrorismo hay testimonios

en un conflicto eso lo van a ver nuestros chicos y chicas en las escuelas chicos de quince y dieciocho años que no vivieron el terrorismo que su fundamental referencia sobre lo que hemos padecido en euskadi va a ser lo que le enseñen en la escuela señor lehendakari mis hijos que van a la escuela pública y perdóneme la referencia personal si ven esos vídeos van a pensar que su padre tuvo una cuota de responsabilidad en que le quisieran matar

es que los testimonios que justifican y que avalan a eta las críticas son múltiples hay críticas que van desde la omisión de testimonios relevantes que dan una foto muy real de lo que hemos padecido en euskadi hay críticas que

que viene a justificar que como estábamos en un conflicto eta era una expresión más pero es que el problema fundamental es que hay gente que en esos vídeos le preguntan un exdirigente de sortu o bildu usted que autocrítica está dispuesto a hacer

estoy dispuesto a hacer una autocrítica que consiste en cuando sufríamos no fuimos lo suficientemente sensibles a lo que sufrían los demás esto es inaceptable

ético que queremos que enseñe nuestra escuela a nuestros chavales señor lehendakari con toda serenidad

modifíquenla es inaceptable y es una vergüenza y sobre todo es preocupante porque nuestros chicos insisto estos que no han vivido el terrorismo que afortunadamente no han tenido que vivir esa euskadi no pueden creer que lo que aquí pasó fue culpa de todos y que nos

y que bueno esto de asumir responsabilidades es muy relativo
si el de enfrente la asume yo también como si todos tuviéramos la misma responsabilidad no es justo eskerrik asko sémper jauna lehendakari jauna zurea da hitza

se puede mejorar y estamos en el momento de hacerlo el momento de recoger aportaciones analizar el conjunto de la unidad didáctica

entre los cuales usted también participó señor sémper el momento de escuchar a los autores a los autores de la unidad didáctica a partir de ahí llegará el momento del contraste con una experiencia piloto

deslegitimador del terrorismo de eta y la violencia con el programa adi adian además

han visitado memoria plaza escuchando el testimonio de víctimas del terrorismo y la violencia

y herenegun desde la perspectiva histórica son complementarios comparten el mismo objetivo de deslegitimación del terrorismo y la violencia

templanza con perspectiva transparencia y contención y también con receptividad hacia las aportaciones y acepto que el material se puede mejorar ahora bien

al instituto gogora al departamento de educación y a las personas expertas que han trabajado en este material de pretender legitimar o blanquear el terrorismo de eta eso es

falso y es justo lo contrario y le leo la propuesta de conclusión del material didáctico que espero que se la haya leído la de la unidad didáctica del material didáctico y dice todo lo peor que nos ha pasado en sesenta años tiene que ver con dos claves una no haber respetado los derechos humanos creyendo que el uso de la violencia era lícito

que la dignidad humana la vida y los derechos humanos y dos no haber respetado el pluralismo no aceptar ni respetar a quien es diferente o piensa de otro modo y sentirse dueño de toda la verdad dogmatismo de legitimar o blanquear todo lo contrario deslegitimar todo tiene un límite y han ido demasiado lejos con sus acusaciones y juicios de intenciones señor semper yo usted dijo para la convocatoria de alsasua si algo tiene que hacer la política es serenar los ánimos y enfriar el ambiente y no encender ánimos estamos avanzando hacia la convivencia

día nos llega de tantas personas en especial de tantas mujeres por el creciente número de episodios graves muy graves de violencias machistas esta preocupación está basada en datos objetivos y reales que durante años

desde elkarrekin podemos una vez más nos hacemos eco de esa preocupación y la traemos aquí porque entendemos que es un asunto político de máxima prioridad para la convivencia la igualdad y la justicia del cien por ciento de la ciudadanía en el día a día de este parlamento llevamos las políticas feministas a todas las agendas del pleno comisiones y ponencias

y las violencias machistas se están abriendo camino para ocupar el lugar prioritario que le corresponde en la agenda política de euskadi

muchas veces anónimo y silencioso de tantas mujeres que en este parlamento en la academia en las calles en los sindicatos en todas las instituciones vascas vienen trabajando

la ciudadanía desde elkarrekin podemos hemos presentado cuarenta y cinco

a las que tenemos que sumar todas las iniciativas específicas para la igualdad y también todos aquellos procesos parlamentarios en los que hemos incorporado a través de propuestas concretas la necesidad y exigencia de que la perspectiva de género

todas y todos desde el rol que tenemos cada una debemos impulsar todas las medidas que sean necesarias para redoblar esfuerzos queremos un parlamento y un gobierno que den señales claras inequívocas más allá de declaraciones titulares anuncios oportunistas o reacciones de condena cuando suceden feminicidios

del número de denuncias así lo afirman desde el consejo general del poder judicial el departamento de seguridad y la fiscalía han aumentado el número de denuncias por violencia de género ejercida por pareja o expareja y también ha crecido el número de denuncias por violencia ejercida por desconocidos

que recoge datos de todas las policías estatales y autonómicas y en euskadi las agresiones sexuales con penetración han crecido un cuarenta por ciento entre enero y septiembre el resto de delitos relacionados con la libertad sexual han aumentado también un treinta y dos coma tres por ciento

ya que sumando agresiones y abusos se llega a la cifra de cuatrocientos noventa y cuatro un treinta y tres coma cinco por ciento más que el año pasado y el número de denuncias aumentan pese a que los sistemas de información deben ser revisados como acordó este parlamento a iniciativa de nuestro grupo

por violencias machistas están dispersos bajo conceptos diferentes

y ante esto qué hacen ustedes piloto automático el aumento de denuncias se puede explicar por una mayor conciencia social y porque cada vez tenemos más

en este caso celebramos el aumento de denuncias reconocemos todos los avances logrados que se lo debemos en primer lugar a toda la historia de lucha reivindicaciones y propuestas del movimiento feminista y de las mujeres

importantes para sensibilizar y visibilizar sin embargo las instituciones vascas tienen que estar preparadas no solo para sensibilizar y concienciar que eso está muy bien también para hacer una intervención integral que garantice la prevención

la atención la protección y la reparación queremos una euskadi feminista

y estamos convencidas de que la mejor estrategia para la prevención de las violencias

y resultados en absolutamente todos los ámbitos de la vida las violencias machistas se ejercen hacia las mujeres a lo largo de todas sus vidas y en las diferentes

de forma diferente en euskadi según datos oficiales de las cuarenta y uno mujeres asesinadas entre los años dos mil dos y dos mil diecisiete el treinta coma noventa y cinco por ciento tenían más de cincuenta años sin embargo las estadísticas nos dicen

las mujeres mayores se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para llevar adelante proyectos de vida libres de todo tipo de violencias ser

es un factor de alto riesgo de sufrir abuso y malos tratos pero además a esto hay que sumarle las violencias machistas las mujeres mayores tienen vidas cotidianas que son el resultado de acumular todas las desigualdades que han experimentado a lo largo de su vida décadas de roles de género impuestos años de trabajo invisible y no reconocido en los hogares la división sexual del trabajo

con un porcentaje elevado de jornadas reducidas contratos a tiempo parcial en sectores generalmente peor pagados la precariedad del sector de los cuidados

y en algunos casos historias de vida y presentes marcados por las violencias machistas en el ámbito del hogar son mujeres muchas que han sufrido y sufren maltrato durante años

hablamos de mujeres mayores e invisibles apenas hay datos

algunas sin ser conscientes y sin posibilidad de rehacer sus vidas

al respecto hemos constatado que las mujeres mayores son más invisibles y denuncian menos por muchas causas en primer lugar porque la propia sociedad seguramente también o todavía no reconoce que las mujeres mayores también sufren violencias machistas en casa en la calle en las residencias en los bailes en benidorm o en los parques y plazas de nuestros pueblos no no aparecen en los imaginarios sobre violencias machistas además algunas durante años

por los hijos por el qué dirán por el que hay que aguantar y después continúan en silencio por los nietos por no dar disgustos

porque no tienen recursos económicos propios porque les tocó vivir unos años en los que las violencias machistas estaban naturalizadas y justificadas

a los mandatos de género y a una sociedad abiertamente patriarcal y sin posibilidad de la menor crítica y muchas no denuncian porque tiene que ver con unas creencias unos conocimientos propios de una cultura

es por eso que las circunstancias sociales y personales de muchas mujeres mayores les hace ser un grupo con un mayor riesgo de sufrir violencias machistas y también mayores dificultades para salir

específicas están previstas para prevenir y proteger todas las formas de violencias machistas que afectan a las mujeres mayores eskerrik asko

de que las mujeres mayores pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad en términos generales

siendo así y reiterando la relevancia del tema me va a permitir una precisión sobre la cifra que recoge en su interpelación utiliza el dato del

ha hablado después del treinta coma noventa y cinco para poner de manifiesto que este problema tiene más incidencia entre las mujeres mayores de cincuenta y ocho años ahora bien le recuerdo que las mujeres mayores de cincuenta y ocho años representan más del treinta por ciento del total de nuestra sociedad por lo tanto

sí como le he dicho al principio que puedan estar en una situación de mayor vulnerabilidad en todo caso en el problema de la violencia machista no hay edades sobre las que actuar todas las mujeres tengan la edad que tengan deben recibir

y en cuanto a las mujeres mayores es cierto que imaginamos en algunos casos una experiencia de socialización en un contexto social político y cultural muy diferente al actual

no nos puede llevar a concluir que todas las mujeres mayores puedan requerir una intervención especial esto podría suponer una revictimización de las mujeres mayores y un retorno a estereotipos indeseados por el contrario

son fuente de aprendizaje para generaciones futuras y por ello sí tenemos claro que el empoderamiento de las mujeres mayores es fundamental para la prevención de la violencia una idea en la que me detendré más adelante

realidades primero porque el rechazo a la violencia que se ejerce contra las mujeres en sus diferentes formas y manifestaciones es cada vez mayor desde todos los ámbitos segundo porque se ha extendido socialmente el reconocimiento de que la pedagogía de la igualdad es clave para la prevención tercero porque

implementando las medidas necesarias para prevenir y atender de forma integral a todas las víctimas hasta su completa recuperación

las mujeres mayores reconozcamos por lo tanto el esfuerzo realizado y las medidas que se han adoptado lo que no impide reconocer que las mujeres jóvenes y mayores siguen sufriendo esta vulneración de derechos humanos el problema es relevante lo son los objetivos identificados que se han ido adoptando para paliarlo y me remito al séptimo plan de igualdad y le recuerdo que entre sus objetivos incluye reforzar y consolidar la prevención de la violencia contra las mujeres aumentar la

aumentar el número de mujeres víctimas de todo tipo de violencia que acuden o que acceden de forma temprana a los servicios y recursos con especial atención a aquellas para las que son

la accesibilidad y disponibilidad del sistema de atención incluyendo diferentes variables entre esas variables se encuentra la edad por lo que el objetivo de mejorar la accesibilidad del sistema de atención a las personas mayores ya está contemplado en el plan de igualdad vigente además de las ayudas el plan apunta al objetivo que usted mencionaba ese de sensibilización y de prevención

establece que las administraciones públicas vascas en el ámbito de sus competencias y de forma coordinada han de realizar campañas

y prevención de la violencia contra las mujeres y los órganos competentes en materia de formación del personal de las administraciones públicas en colaboración con emakunde

a las necesidades de las y de los diferentes profesionales con implicación en la intervención en materia de violencia contra las mujeres esto es lo que dice la ley aurten

gazteak eta helduak jaso behar dute gure babesa laguntza eta elkartasuna en euskadi por lo tanto contamos con una arquitectura para favorecer la igualdad hablamos sí de sensibilización y prevención porque todos los programas

y la sensibilización social se convierten en herramientas de prevención de la violencia contra las mujeres

son ejemplos que tienen en cuenta la diversidad de las mujeres incluyendo las mayores en el ámbito de la formación del personal contamos con el programa formativo jabetuz dirigido a

el objetivo es impulsar una perspectiva común consensuada

tomando el empoderamiento de las mujeres con eje principal de la formación y de los profesionales contamos también con un procedimiento específico y muy completo dirigido a la prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a las personas mayores hablo de realidades en marcha de una administración pública comprometida con la igualdad he citado con anterioridad el empoderamiento y es uno de los ejes principales del séptimo plan

es una de las herramientas fundamentales para prevenir la violencia contra las mujeres un empoderamiento que en el caso de las mujeres mayores se produce especialmente en el plano personal

y protagonismos en términos o de esta forma alcanza una vida autónoma y pueden participar en términos de igualdad en el acceso a los recursos

esta es una realidad que ha sido analizada en profundidad por emakunde el estudio denominado la autonomía de las mujeres mayores en el país vasco y su contribución a los procesos del empoderamiento

que una de cada cuatro mujeres de más de sesenta y cinco años ha comenzado una actividad nueva en su actual estatus de persona mayor este dato pone de manifiesto

de continuar estando activa individual y socialmente por lo tanto señora arana no partimos de cero tampoco con el tejido asociativo destinamos más de seiscientos mil euros anuales a las asociaciones de mujeres para trabajar el empoderamiento y la prevención de la violencia

órgano de interlocución de emakunde decidieron profundizar en el conocimiento de las temáticas de interés de las mujeres mayores dada su importancia capital más realidades

emakunde apoya los proyectos que contribuyen al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia a través de dos líneas de subvención dirigidas a las asociaciones de mujeres

las asociaciones de mujeres llevan a cabo una labor encomiable como también las escuelas de empoderamiento local y no podremos por lo tanto agradecer en su justa medida

evidencia que emakunde las asociaciones de mujeres y el conjunto del gobierno vasco tenemos muy en consideración la realidad de las mujeres mayores el problema persiste sin duda pero solo conseguiremos superarlo si seguimos avanzando y reforzando las medidas que emakunde los departamentos del gobierno el resto de instituciones y las propias asociaciones vienen planteando

analizando evaluando y mejorando eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

hacer políticas específicas para las mujeres mayores no es revictimizarlas

recursos necesarios para poder salir de las violencias las mujeres somos diversas y hay fenómenos particulares por edad no es igual la intervención a una

de sesenta hablamos de respuestas adaptadas no de revictimizar y el informe al que usted ha hecho referencia de emakunde es del dos mil doce un poco obsoleto no le parece

una vez más escuchamos una retahíla de planes programas con nombres fantasía que pueden llenar titulares y páginas

ofrecen simples soluciones a problemas complejos ustedes quieren tapar el sol con un dedo

que se hace de la igualdad y la erradicación de las violencias machistas en su gobierno desde elkarrekin podemos consideramos que esta vulneración sistemática

ustedes siguen como ya le he dicho muchas veces con el piloto automático

otra vez comprobamos que el discurso del gobierno y las expresiones de prioridad no se corresponden con los recursos asignados para continuar avanzando hacia la igualdad de mujeres y hombres analizados los presupuestos seguimos pensando

en los que la prioridad sea erradicar las desigualdades y las violencias machistas que sufrimos las mujeres

constatamos que las más altas autoridades del gobierno tienen la responsabilidad pendiente de adquirir más formación sobre lo que es hacer política pública

ustedes hablan de aumento de los presupuestos para igualdad gran titular debido a la inclusión de partidas para la conciliación

y si analizamos con más detalle vemos que esas partidas son de ayudas que por su diseño producen un efecto negativo en las mujeres totalmente sorprendidas

artolazabal que resulta que según ustedes mismos aumentan la brecha salarial alucinadas

informes que el propio gobierno elabora se afirma en dos mil dieciocho y este mismo año que estas medidas para la conciliación

según el informe es una constatación que las mujeres son las que se acogen principalmente a estas medidas y son por lo tanto quienes ven mermadas sus oportunidades en el ámbito laboral ahondando aún más en la brecha salarial entre mujeres y hombres y el mismo departamento incluye una partida para promover la corresponsabilidad que ustedes llenan de titulares

podríamos tenerlo en dos mil diecinueve así que los presupuestos para igualdad se inflan con ayudas que ustedes mismo califican de perversas o con ayudas

para que cada mujer se busque la vida como pueda las políticas feministas son muchísimo más que ayudas individuales así que

y ponemos entre interrogantes todos los anuncios mediáticos más aún cuando vemos como ya he dicho partidas que aumentan la brecha salarial como pertinentes a la igualdad o partidas que no se van a ejecutar porque no hay decreto curioso cuanto menos señor urkullu desigualdad y violencias machistas son dos caras de la misma moneda

no hay manera de avanzar en la erradicación de las violencias machistas para las mujeres mayores

para la prevención y protección de violencias machistas es una propuesta de actuación del séptimo plan que habla de investigar

de cuatro años le parece esto suficiente sin duda hay que redoblar bueno hay que triplicar esfuerzos porque los datos que tenemos revelan

una realidad invisible en la que hay que invertir de forma urgente

mayores para salir de la violencia todo mi reconocimiento a ellas porque ellas no fueron ni son mujeres pasivas

de las pensionistas y el ocho de marzo esas mujeres con diferentes estrategias lograron transmitir a la siguiente generación de mujeres

mayor autonomía y mayor igualdad y justicia son un eslabón fundamental en la historia del movimiento feminista

y absolutamente hostiles para las mujeres eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora arana con el debido respeto me parece que ha venido usted a hablar de todo menos de lo que es la pregunta de interpelación qué medidas específicas están previstas

mayores se lo he explicado en la primera intervención hace usted referencia al informe del año dos mil doce y ha utilizada para la justificación de la pregunta en la interpelación el periodo

dígame usted si no está obsoleto mire

este país tiene una experiencia y una trayectoria este país ha demostrado

eso sí para usted nunca nada es suficiente señora arana

nunca le he escuchado plantear un modelo que se haya demostrado más eficaz o mejor que el que aquí se ha desarrollado durante treinta años y se ha desarrollado entre las instituciones emakunde y las asociaciones de mujeres

eso no quiere decir que no debamos mejorar señora arana por supuesto que sí tenemos que avanzar y vamos a seguir haciéndolo en línea con las políticas internacionales

vamos a seguir mejorando las políticas de igualdad en todos los ámbitos gobernanza cambio de valores autonomía y empoderamiento de las mujeres prevención asistencia y sensibilización social este trabajo constante y perseverante marca de la casa emakunde es la vía más eficiente

de esta intolerable violación de los derechos humanos vamos a seguir también actuando en el corto plazo articulando medidas y recursos para la protección y atención integral a las víctimas

hemos asumido el compromiso con estos objetivos la coordinación formación sensibilización y evaluación constante son herramientas indispensables para hacer frente al fenómeno de la violencia contra las mujeres y a la desigualdad existente en nuestra sociedad

un ejemplo el análisis de la base de datos de atención a las mujeres atendidas en los recursos del gobierno en los últimos tres años actual en los últimos tres años no dos mil doce

constata que la puerta de entrada principal de las mujeres mayores a los recursos se realiza a través de la atención primaria en el ámbito de la salud

un avance en la prevención y detección de la violencia en las mujeres mayores otro ejemplo en el proceso participativo de elaboración del séptimo plan de igualdad

reitero no sé dónde se ubica usted las asociaciones de mujeres tomaron la decisión de realizar sus aportaciones al eje vidas libres de violencia contra las mujeres y resaltaron la omisión de cuidados especialmente en el caso de mujeres mayores

de igualdad y un último ejemplo señora arana emakunde está realizando una evaluación para la mejora en los servicios que se ofrecen a las mujeres víctimas de violencia incluidas las mujeres mayores participando en un programa global sobre servicios esenciales para las víctimas

unidas y esto lo está haciendo emakunde señora arana son ejemplos de un país comprometido con la igualdad que actúa que evalúa y que refuerza para mejorar así lo venimos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo

deben recibir toda la atención ayuda y solidaridad en contra de toda violencia machista señora arana si usted se ha quedado contenta con una retahíla de frases hechas y lugares comunes que utiliza siempre nosotros como gobierno y emakunde seguiremos trabajando para

en el mundo de la violencia contra las mujeres el trabajo por la prevención y también la erradicación de la violencia contra las mujeres eskerrik asko eskerrik asko

inguruan gracias señora presidenta buenos días a todas y todos

nahi izateak herri honen zati handi bat batu du porque aquí todas y todos queremos vivir mejor pensionistas mujeres

autogobierno es para eso porque con españa no vamos a ninguna parte porque es un país antidemocrático que no avanza peor aún que retrocede eso es lo que provoca fractura social no el anhelar un mayor autogobierno porque aspirar a tener una relación de igual a igual con el estado español es aspirar a vivir mejor eso no es fractura señor urkullu eso es lo que nos une precisamente

en presencia también reitero de otras y otros representantes de este parlamento de mi intervención

y a partir de aquí una pregunta planteó la situación de cataluña de cataluña y afirmé que compartimos una misma realidad nacional

evolución histórica ciento cuarenta años de concierto disposición adicional primera de la constitución española sobre los derechos históricos y disposición

de los territorios del pueblo vasco influencia del terrorismo y la violencia y vía para la normalización de la convivencia

de una respuesta política mencioné la directiva de claridad en europa la asunción de la realidad plurinacional en el estado y por último afirmé que me preocupa el riesgo de fractura social

de las instituciones de autogobierno lo hice en mis escritos desde el veinte de septiembre del año pasado de octubre del año pasado el riesgo de fractura social no está vinculado a la reclamación de un mayor autogobierno el autogobierno es factor de cohesión social ha de ser factor de cohesión social el riesgo de fractura social está vinculado al desdén al menosprecio al desprecio

gracias señora presidenta buenos días a todos bien tal como ponemos de manifiesto

esta cámara llegó por unanimidad a un acuerdo a un acuerdo en el que se instaba al gobierno vasco

en el año dos mil dieciocho el estudio informativo de la línea cuatro del ferrocarril metropolitano de bilbao garantizando un proceso participativo

del ejercicio siguiente del ejercicio dos mil diecinueve una consignación económica suficiente para la elaboración del proyecto constructivo del tramo moyua rekalde

más de seis meses desde ese acuerdo nosotros queríamos hacérsela con anterioridad

pero bueno se la voy a hacer hoy queríamos saber si se había dado y cómo se había dado cumplimiento por parte del gobierno vasco al acuerdo que esta cámara adoptó por unanimidad de todos los grupos

si usted señora consejera si a ustedes señores del gobierno lo que apruebe este parlamento les es indiferente

el tren de alta velocidad parón reconocido por usted y provocado por la llegada al gobierno de españa

pero usted señora consejera le señalaba a mi compañera

que llevaba un retraso enorme y decía que el estado español tenía muy poca intención de hacerla

señora consejera los vecinos de rekalde pues dirían manda no voy a decir la frase que dijo el señor trillo pero es perfectamente aplicable en este caso pero manda

el gobierno vasco y usted señora consejera hablando de retraso de una infraestructura y hablando de intención pues bien hablemos cuánto tiempo llevan los vecinos de rekalde esperando la línea cuatro del metro cuánta voluntad ha mostrado su gobierno el gobierno vasco

todo y nada llevan esperando todo el tiempo del mundo

que ha mostrado este gobierno es la nada la nada y sé que el cronograma lo he expuesto ya en muchísimas ocasiones

los vecinos querían que la línea tres llegara hasta rekalde pero se les dijo que no en dos mil ocho se hizo público el trazado preliminar de esa línea cuatro entre moyua y rekalde y si usted se va a retrotraer al proyecto

entonces más tiempo se dijo que en dos mil doce empezarían las obras dos mil dieciséis estarían acabadas pues bien

y más de diez años después de hacerse público ese trazado y siguen igual que al principio sin nada y lo que es peor viendo como

no son una prioridad para el gobierno del partido nacionalista vasco y no es una cosa que digan ellos

ustedes ustedes han puesto de manifiesto en esta cámara que no es una prioridad en dos mil catorce ustedes lo dijeron que esa línea cuatro no era una prioridad por boca de la señora oregi que

y en qué punto estamos pues como en el dos mil ocho no peor

en primer lugar porque los vecinos de rekalde en este momento ya no saben si van a tener metro o no ya están como para pedir plazos verdad como para decir cuándo va a empezar la obra

si lo van a tener porque usted señora consejera el otro día en la presentación del presupuesto qué dijo fue muy cuidadosa en sus palabras

para el año dos mil diecinueve habrá un estudio informativo de todo lo que van a ser las necesidades

de bilbao no habló del estudio informativo del tramo moyua rekalde no usted habló de las necesidades

sí que habló directamente de este tramo hablo directamente del tramo moyua rekalde pero usted en la segunda intervención volvió a ser

tan propia de los nacionalistas pues en esa segunda volvió a hablar de la atención a rekalde irala y todos los barrios del sur pero tampoco mencionó en ningún momento el tramo moyua rekalde y lo hizo a nuestro juicio totalmente a propósito y no solo lo creo yo lo creen también los vecinos de rekalde que están indignados con sus palabras del otro día que han mandado a los medios una nota de prensa y que han anunciado

por eso yo le pregunto señora consejera esa información que usted anunció en los presupuestos ese estudio informativo es el estudio informativo para el tramo

van a tener los vecinos de rekalde vaya por delante que en todo caso señora consejera ha incumplido el mandato de esta cámara porque esta cámara acordó que ese estudio tenía que estar realizado en el dos mil dieciocho porque su partido

votó en esta cámara a instar a su departamento a que este año hiciera el estudio informativo y supongo que votaría con su anuencia porque ya sabemos que para votar algo

entonces por qué votaron que sí para no quedarse solos para quedar bien pero sin ninguna intención porque ustedes no lo iban a cumplir

y usted le contestó que el retraso estaba en la no realización del estudio informativo y que entre marzo y junio el gobierno del señor rajoy

más que tiempo suficiente o sea el gobierno central tenía tiempo y el gobierno vasco no el gobierno central entre marzo y junio puede hacer el estudio informativo y usted entre abril y diciembre no son más listos

gobierno de españa que el gobierno vasco porque ya le digo la iniciativa fue aprobada

o sea que aplicando sus mismos criterios que le dijo a la señor lópez de ocariz ha habido tiempo ha habido pero no para el gobierno vasco parece que no ha habido tiempo y usted señalaba le vuelvo a repetir

de todo lo que van a ser las necesidades o que va a suponer asumir las necesidades de transporte público en rekalde irala y

qué es ese estudio volver a reflexionar volver a pensar cuál es el mejor transporte para rekalde utilizar

desterrar todo lo analizado hasta ahora todo lo reflexionado hasta ahora y sí le pido una cosa señora consejera no nos vuelva hacer el publirreportaje

ya sabemos que su departamento tiene muchísimas obras en marcha y muchísimas infraestructuras en marcha muchas pero yo

decirnos cuál es su prioridad y si en esa

el departamento los vecinos de rekalde los vecinos de irala los vecinos del sur de bilbao

están en esa prioridad o no sin son prioritarios o no

eso es lo que le pregunto no me vuelva a repetir

y ya por extensión me cuente todas las de euskadi yo le pido

que viene en el dos mil diecinueve el estudio informativo del tramo moyua rekalde y el proyecto constructivo van a ser una realidad sí o no

lo comenté el miércoles y lo reitero y usted lo ha leído muy bien estudio informativo del mejor transporte público que si

entiendo o se sobre entiende que es ferroviario que es el mejor transporte ferroviario posible con condiciones y calidad de metro

sino que tiene calidad de servicio y frecuencia suficiente esas son las premisas con las que trabajamos una vez analizado el estudio informativo correspondiente para el cual decía hay un millón cincuenta mil euros en la partida de estudios y proyectos de

por qué hablamos de ese estudio informativo en este momento qué inputs tenemos que tener en consideración

por una parte la llegada y la solución definitiva de la llegada del tren de alta velocidad a bilbao con una solución ya acordada y eso significa que

según lo acordado en marzo de dos mil diecinueve pero existe ya una solución que llega abando de una determinada manera además existe una línea ferroviaria y usted lo sabe bien de cercanías

entre santurtzi y abando otra vez en ancho ibérico y que requiere también una modificación o una nueva estación en abando y eso significa también que hay que considerarlo

que discurre en el entorno además de rekalde e irala y se espera inminente transferencia de acuerdo con el obligado cumplimiento

eso también es algo a considerar y existe otra línea además sobre la que existe una permanente reivindicación por parte del gobierno vasco de transferencia entre bilbao y la concordia y eso también modifica esa situación o si no la modifica al menos obliga a considerar qué servicio se puede dar por ahí e integrarlo en una solución general y también

sostenible elaborado por el propio ayuntamiento de bilbao en ese estudio informativo qué debe haber pues debemos tener en cuenta

estudios de rentabilidad económica social medioambiental y sobre todo analizar todos los tipos de transporte ferroviario que existen que den el mejor de los servicios como transporte público ferroviario y quiero insistir con frecuencia y calidad eso es lo prioritario para todas las personas usuarias de transporte público

seleccionar y solucionar ese problema de acuerdo con las mejores alternativas por eso

es cierto que cuando se elabora el estudio informativo anterior y luego lo analizaré en detalle existían algunos condicionantes y algunas incógnitas que hoy están despejadas

el cómo y el cuándo de la llegada del tren de alta velocidad a abando está despejada

condiciona la solución definitiva por tanto

y nuestro compromiso es de poderlo licitar antes de final de este año para que se ejecute en el dos mil diecinueve qué hemos hecho hasta ahora en esta línea

dieciocho de diciembre de dos mil doce y no me voy a retrotraer hasta más allá hasta más atrás se

la información pública del estudio informativo de la línea cuatro sobre ese estudio informativo además se tuvieron que completar y usted recordará perfectamente evaluación de impacto ambiental

el estudio informativo se tuvo que readecuar porque requerimientos ambientales habían sufrido algunas modificaciones de acuerdo con la ley veintiuno barra dos mil trece y el trabajo requirió una readecuación y una puesta al día y en octubre de dos mil dieciséis

y tenía plazo de finalización julio de dos mil dieciocho no está finalizado porque se ha pedido ampliación de plazo hasta diciembre de dos mil dieciocho por qué se ha pedido

del proyecto constructivo de la elaboración de ese proyecto constructivo y como usted sin duda sabe se ha producido una modificación de la solución constructiva prevista en lo que hace referencia a la estación en moyua la estación en moyua en el estudio informativo estaba prevista como lo que se denomina cut and cover es decir abrir la estación y volverla a cubrir después

que es posible hacerlo en caverna de tal manera que no se moleste para nada

la plaza moyua por tanto eso significa una modificación sustancial y se ha visto que es mejor y además con menos recursos económicos se podría realizar esta nueva situación hace que por sí misma sin ninguna otra alteración requeriríamos reelaborar el estudio informativo puesto que ya lo habíamos reelaborado como consecuencia de las condicionantes de la evaluación de impacto ambiental

de cómo se ejecuta ese proyecto constructivo nos obliga a retrotraernos y a realizar el estudio informativo completo de ahí que junto con este condicionante y lo que le hablaba de la modificación que se ha producido en bilbao nos planteemos el volver a hacer un estudio informativo completo de la solución de la llegada a rekalde

todas las personas todos los bilbaínos y bilbaínas que están

por tanto respecto a esos estudios y proyectos estamos finalizando ya constructivo y me va a permitir que le diga que ante este condicionante sí es cierto que observando que se estaba produciendo esta modificación en el proyecto constructivo en

hemos retrasado y soy consciente de que así lo hemos hecho la elaboración del proyecto constructivo

el de moyua rekalde pero precisamente porque teníamos que elaborar un estudio informativo y

esa ha sido la causa por la cual en este momento estamos finalizando

y tenemos que reelaborar el estudio informativo a la vista de todas estas modificaciones creemos sinceramente que lo tenemos que hacer así para dar una solución adecuada y no nos estamos planteando no dar un buen servicio

no dar un servicio de calidad y con la frecuencia adecuada el mejor servicio a todas esas personas viviendo en rekalde viviendo en irala y en sur de bilbao pero necesitamos

todo ello se retrasa es cierto pero creo que

la mejor posible como solución y por otra parte que nos permita garantizar que los recursos que utilizamos lo hacemos de la mejor manera posible también eskerrik asko

gracias señora consejera gracias por el no por el publirreportaje de otras obras pero sí ha hecho publirreportaje de un tramo

y tengo que reconocerle la habilidad verdad si usted estuviera dando una

pues a lo mejor los periodistas no tienen opción a preguntas se la hubiera colado pero como esto es una interpelación verdad

dar el mejor transporte público transporte ferroviario con calidad y frecuencias con

es desterrar el metro a rekalde es lo que está haciendo

salvar la cara para las elecciones municipales y forales es lo que está intentando porque claro los vecinos ya le digo llevan veinticinco años esperando el metro

porque es lo que está diciendo lo que subyace en el fondo es lo que está diciendo que no van a tener metro usted me habla

ya le estoy diciendo qué va a hacer con los barrios altos qué va a hacer con los barrios altos a los que sí estaba previsto que llegase el metro qué va a hacer un tranvía

porque transporte ferroviario con frecuencias también puede ser va a volver a sacar el tranvía qué va a hacer va a poner lanzaderas como en galdacano una línea cinco que los tiene contentos a los vecinos eso es

poníamos aquí sobre la mesa es que tenía que haber un proyecto participativo escuchando a los vecinos hasta ahora no los ha escuchado porque estoy convencida

le hubieran dicho que ese nuevo estudio no les gusta nada aquí esta una nota de prensa que mandaron ayer de sus palabras del otro día

esto es el gobierno de las personas escuchar a estos vecinos los va a escuchar

no nos lo venda ahora como es que claro como antes iba en caverna y ahora va a ir

que no que usted lo que no quiere es hacer el metro a rekalde pero dígalo claramente y entonces ahora como tiene la línea de feve entonces va a volver a hacer un estudio informativo de qué es lo que va a hacer

interpelación usted me habló de la autoridad de la movilidad de bizkaia ahora ya

es el estudio informativo de las necesidades de cómo vamos a cubrir las necesidades del servicio público

otra cosa es que usted eso no le guste y haya decidido que no hay metro a rekalde si es tan fácil como eso

no va a haber metro a rekalde va a haber otro tipo de transporte pero metro no

es así de sencillo señora consejera decirlo no va a haber metro

de la calidad de la frecuencia y de una cosa que usted suele mencionar que es la rentabilidad económica mire

desde luego tiene que tener viabilidad económica la rentabilidad social también es muy importante

los barrios de bilbao son los que más diferencia en renta tienen los que más diferencia tienen de toda euskadi

y la renta por ejemplo del peñascal que es la última le estoy hablando de las dos primeras y de la última hay una diferencia de entre treinta mil treinta y tantos mil y doce mil diezcero

fíjese las diferencias vertebrar bien bilbao significa acabar con esas diferencias y desde luego esa vertebración tenía que haberse realizado hace mucho tiempo hombre claro que reconoce

evidentemente que ha habido retrasos pero es que va a seguir habiendo retrasos y usted no ha cumplido lo que esta cámara le dijo ni ha escuchado a los vecinos ni ha hecho el estudio informativo que se le solicitó y lo que va a hacer en el año dos mil dieciocho tampoco es lo que esta cámara le solicitó porque usted

como lo han dicho en otras instituciones que aprueben lo que quieran que el metro no se va a hacer eso lo han dicho ustedes en los pasillos de otra institución como son las juntas generales de bizkaia y eso es una realidad

sean valientes digan no va a haber metro eskerrik asko llanos andrea tapia andrea zurea da hitza

ahora bien le voy a preguntar qué es metro qué es metro

metro es un servicio ferroviario que atienda a determinado número de personas alrededor de ochenta millónes

y que tenga una frecuencia adecuada de cinco minutos o menos eso es un metro y eso es lo que funciona en bilbao en la línea uno dos y tres

y además cualquiera de ellas va sobre unas vías preexistentes y eso se podría haber hecho utilizando un transporte vía

más pesado o de otro tipo sí o no sí verdad eso es un metro por tanto

un poco más pesado que un tranvía es cierto con unas frecuencias determinadas y sobre vía en este momento ferroviaria eso es lo que es un metro y a partir de ahí podemos discutir todo lo que usted quiera

la mejor calidad de servicio sobre un transporte ferroviario y con esa calidad y ese servicio de una frecuencia de cinco minutos por tanto nunca

vertebrar el territorio vertebrar el territorio se vertebra con muchas medidas y vertebrar el territorio depende del número de viajeros se vertebra

se vertebra con un autobús se vertebra con un autobús algo mayor de más metros atendiendo a más vecinos se vertebra con un tranvía

se vertebra con todo tipo de transporte y no me haga demagogia con eso por favor vertebración de territorio significa

en diferentes lugares de este país tengamos unas oportunidades similares eso es vertebrar el país y no que el metro llegue a todas las esquinas eso es vertebrar el país que todos tengamos unas oportunidades de transporte público similares en similares condiciones de calidad y de servicio vertebrar el país me está hablando de si escuchamos a los vecinos o no escuchar no significa hacer lo que todos o una parte de ellos quieren

atender lo que se está solicitando y buscar la mejor de las soluciones para dar servicio a eso que se está solicitando eso es lo

el cien por ciento de acuerdo suele ser prácticamente imposible cuando están implicadas muchas personas y quiero insistir estamos trabajando en la mejor de las soluciones

a usted o no en determinadas circunstancias con un proyecto constructivo en marcha un estudio informativo y una forma de trabajar en obras públicas

y por mucho que usted quiera que lo haga para mañana hay circunstancias que hacen que tenga que modificar y me tenga que retrotraer le gustará o no lo que es el proyecto constructivo en caverna o no es la circunstancia que se ha dado

y es así no es una excusa es una realidad y lo tenemos que hacer así para cumplir todos los requerimientos y las elecciones

yo creo que todavía a este gobierno vasco les quedan otros dos años y tenemos mucho trabajo por hacer antes que ponernos a pensar

tenemos trabajo por hacer y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible con responsabilidad y con poca demagogia eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

que está articulando su gobierno una alternativa para que la naval siga adelante

luego hablaremos de ellas pero otras creo que están bastante claras y que en ese acuerdo hay aspectos fundamentales que su gobierno está incumpliendo se proponía crear

en la que participaran las instituciones y los representantes de la plantilla no se sabe nada de esa mesa cuya convocatoria se encomendaba al gobierno vasco

en vez de representantes de la plantilla va a tener que poner unos muñecos de trapo en esa mesa porque plantilla le quedan pocos días o quizás semanas de tiempo para seguir existiendo

se le pedía también un informe para estudiar y respaldar la adquisición publica de activos un informe para estudiar y respaldar la adquisición publica de activos

un informe que ha hecho la asesoría jurídica de su departamento que ni siquiera da cumplimiento al mandato del parlamento pero no porque lo haga mal sino que expresamente en el objeto del informe se habla que el informe sobre las potenciales ayudas

y ustedes que no tienen empacho en gastar miles de euros en campañas de publicidad o encargar asesorías o a consultorías privadas aspectos fundamentales de la acción de gobierno como es la elaboración de planes estratégicos no en este caso recurren a la propia asesoría jurídica del departamento

o una consultoría con experiencia internacional para que se les hiciera lo que se les pedía dónde está aquí el análisis de la perspectiva y de la viabilidad industrial es que no aparece

lo han hecho ustedes mismos para decirse lo que querían oir euskal herria bildu defiende y cree en la publificación de la naval y cree que es legal y si estuviera en nuestra mano sí nosotros fuéramos gobierno estaríamos dando en esa dirección pero no es esa la función que nos ha encomendado la ciudadanía

y nosotros hemos sido respetuosos hemos modulado el discurso y hemos sido discretos

están rotos en torno a la naval por la actitud de este gobierno que ni convoca la mesa tripartita alternativa público privada ni ha presentado el informe que se les había pedido usted señora tapia sigue como decía en otra intervención esperando a godot

porque usted no tiene plan b usted se lo está jugando todo a una única carta esta semana hemos tenido la noticia de la salida definitiva

cerramos la naval no va a haber una intervención pública yo creo que es la hora del rescate público es la hora del rescate público

también con la colaboración de las instituciones públicas es hora del liderazgo público usted tiene que tener un plan b

cumpla su función haga lo que debe compre la naval salve la naval
articule una alternativa pero desde luego no se quede esperando porque el tiempo se nos está agotando eskerrik asko

decía que de acuerdo con la normativa vigente el gobierno vasco estaba dispuesto a tomar una participación pública siempre junto con un inversor privado que es lo que se exige desde la normativa bueno eso es exactamente lo que avala ese informe

en multitud de ocasiones nuestro objetivo inicial era conseguir salvar todos los obstáculos para que el armador

y no ha sido posible es verdad nos hemos dejado la piel en ello y no lo hemos conseguido

articular ese conglomerado público privado para conseguir sacar adelante el astillero ese es el objetivo pero no confundamos por favor

es otra cosa porque el rescate público no es posible cien por ciento público no es posible y vamos a actuar con responsabilidad y con rigor con responsabilidad y con rigor y eso significa que necesitamos público y privado para llegar a una solución y eso no es un rescate y no vamos a confundir términos por favor no me quiero quedar en las palabras pero el contenido es muy importante tenemos que conseguir que exista

con los cuales podamos trabajar ese es el objetivo y esa es la alternativa que tenemos en este momento en la cual estamos trabajando no solo nosotros como gobierno vasco y quiero insistir porque yo creo que es un trabajo que se está haciendo de forma interinstitucional con el gobierno del estado

los tres con la misma voluntad de articular esa solución para que sea una realidad en el

y es cierto que en este momento estamos en la peor de las situaciones no hay draga y tenemos que buscar esa articulación lo más rápidamente posible y sí le comunico lo sabe el comité el próximo lunes hay una reunión gobierno vasco

empezamos a trabajar en el sentido que nos decía la moción eskerrik asko

eskerrik asko el treinta y uno de agosto a más de una le pudo pasar desapercibida la noticia que empezaba a expandirse en los medios de comunicación lanbide alerta del riesgo de perder a una generación entera por la precariedad del empleo juvenil beste behin ere

es necesario realizar esta fase de contraste antes de remitir o publicar ningún informe behin publiko egin ostean kontraste fase bat zabaltzea

pregunta le reitero ya lo que le dije el informe es un documento provisional interno que estábamos trabajando la publicación

ya que era un borrador y no era un informe definitivo y por eso se retiró de la página web

este informe es uno de los muchos que el departamento elabora y analiza ya que el empleo juvenil es uno de nuestros temas principales de trabajo

que toda la juventud también la vasca es uno de los colectivos que más ha sufrido la crisis permanentemente estamos recabando datos no solo en el gabinete técnico sino también

orduan gobernuko estrategia dena es normal habitual que los proyectos y trabajos que se elaboran desde ese órgano se compartan y contrasten con diferentes áreas del gobierno y dadas las fechas en las que nos encontrábamos eso no se hizo

que no había pasado por ese procedimiento de contraste la situación laboral de las personas jóvenes sus posibilidades de emancipación y la prevención de la exclusión en el colectivo constituye para nosotros una preocupación y objetivo que tenemos como gobierno y en el marco de esa responsabilidad

gure politikak egokitzeko por tanto por coherencia es necesario realizar esta fase de contraste antes remitir o publicar ningún informe proyecto

lógico en instituciones y en empresas y es lo que estamos haciendo señora etxebarrieta eskerrik asko

señora etxebarrieta nosotros no enviamos ese informe a los medios de comunicación los medios de comunicación

en lo que el departamento y el gobierno está trabajando para dar oportunidades a los jóvenes la semana que viene como usted bien ha dicho tenemos

expondré y trasladaré los trabajos los informes que en el ámbito de la

realizamos análisis desde el observatorio de la juventud que nos aporta información detallada de los estudios que se realizan desde el órgano estadístico del departamento la información y esos datos

permiten disponer de una imagen más completa para evaluar las tendencias económicas del colectivo y también poder saber las causas de su situación y eso es lo que nos ha servido para poder implementar partidas en el presupuesto en el anteproyecto de presupuestos del año dos mil diecinueve para este colectivo como le decía nos preocupa la situación laboral en la que se encuentra la juventud vasca y por eso estamos trabajando porque

de euskadi se trata de un diagnóstico de situación en el cual se pone de manifiesto las consecuencias de la crisis económica pero yo no quería acabar esta intervención sin decir antes que es verdad que la situación de los jóvenes

pero que el desempleo juvenil en euskadi desde el año dos mil dieciséis y anteriormente va bajando que la cifra de paro de los jóvenes en el año dos mil dieciséis era del veintiséis por ciento

es verdad que tenemos que seguir trabajando pero también es verdad que este gobierno está implementando políticas que favorecen la empleabilidad de los jóvenes eskerrik asko

a los sufridos habitantes de abanto y ciérvana y de muskiz especialmente a los vecinos

porque esta noche no han podido dormir porque petronor estaba de jarana

está muy bien celebrar los cincuenta años pero me parece que se le está yendo un poquito de las manos el asunto y a ver si

pero mientras buscaba mientras enredaba me he encontrado un documento un documento que ha sido muy curioso y que creo que merece la pena compartir

es contundente para la época y trata con bastante precisión lo que tuvimos que soportar y la época es el final del franquismo y ahora imagínense una entrada de nodo por detrás dando un poco de tensión aquí y dice estudios sociológicos sobre la situación social de españa

todas las cuencas fluviales españolas están contaminadas siendo las zonas más afectadas las vascongadas pirineo oriental y cuenca del tajo en vascongadas los vertidos industriales han acabado con casi toda la fauna piscícola de ríos tales como el oria

en algunos de sus tramos el urumea contamina la plaza de san sebastián y el oria ha sido calificado como el río más sucio del mundo

y se quedaron cortos en aquella exposición pues como ve

realmente jodida con un catálogo gigante de suelos potencialmente contaminados con más de catorce mil terrenos contaminados los ríos con metales pesados

los edificios con amianto por todas partes y dedicamos una nimiedad de nuestro presupuesto a corregir todo esto y tenemos graves carencias en la detección y también en la corrección de lo que va apareciendo usted me dirá

que yo no se lo voy a negar pero el caso que le traigo y por eso le he puesto en estos antecedentes viene también de esa época y en concreto

y no sé si se conseguirá apreciar esto es una ortofoto de mil novecientos setenta y siete

en el que se ve a celulosas nervión en iurreta esto es el ibaizabal y en este terreno de al lado que según el catálogo de suelos contaminados son treinta y seis mil metros cuadrados cuatro campos de fútbol se ve

los restos sólidos a este terreno y los líquidos iban directamente al río que era considerado una alcantarilla en ese momento en el ochenta y tres ya a todo color

podemos ver cómo se va acumulando en todo este terreno pues el carbonato cálcico se ven unos charcos oscuros que no se sabe muy bien lo que son y si vemos el año noventa y cinco que ya no es celulosas nervión sino que es smurfit kappa nervión

vemos que estos terrenos se están rellenando y todavía quedan aquí algunas montañas algunas acumulaciones de carbonato cálcico de líquidos y demás

y resulta que si miramos la foto a día de hoy esto lo saqué ayer

vemos cómo al lado de la papelera de iurreta tenemos lo que parece

que está a orillas del rio ibaizabal claro la situación ha mejorado mucho pues yo no lo tengo tan claro porque resulta que de

polvos estas tasas de natalidad como decía kortajarena

resulta que lo que aparentemente lo hemos metido la mierda debajo de la alfombra lo que aparentemente es un lugar verde una zona verde

desde uno vaya a saber cuándo un problema de contaminación de primera magnitud nosotros tuvimos conocimiento de esto en mayo a principios de mayo y quienes nos avisaron de esto nos dijeron que

la diputación de bizkaia y dijimos pues bien que hagan su trabajo pero por si acaso

a ver cómo estaba y resulta que en doscientos cincuenta metros de orilla de rio nos encontramos con esto nos encontramos con esto que nos pareció algo bueno aparte olía fatal olía a papelera un montón

con que había esto como entendimos que el gobierno acababa de ser avisado pues dijimos vamos a darles tiempo vamos a darles tiempo

lo que sí hicimos fue coger una muestra y aquí le traigo la muestra y también cómo no pues la muestra usted me puede decir que estos son

de labaqua tecnalia y le traigo esta muestra que por si no las han hecho

vale el caso es que yo no sé lo que han hecho ustedes pero

que también por supuesto que es toda la contaminación que viene desde tan lejos sino qué está pasando qué está pasando en su departamento y qué está pasando con el gobierno vasco

resulta que seis meses después

nos encontramos con que la situación es exactamente la misma y si bien esa muestra la recogimos en mayo esta muestra la recogimos antes de ayer

pero también le voy a dejar una muestra he traído el bote correspondiente por si usted quiere llevarla a analizar

señor otero permítame en primer lugar una precisión respecto a la formulación de su interpelación pregunta usted por las medidas que nuestro departamento va a adoptar

seguramente se trata de un lapsus quiero pensar involuntario

paso a detallarle qué es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo para asegurar el cumplimiento por parte de la empresa

fijadas en la autorización ambiental integrada siguiendo la normativa vigente sobre prevención y control de la contaminación

remontarnos demasiado la empresa fue sometida el pasado año a una inspección no programada el veintiuno de febrero y a una inspección programada el veintinueve de mayo y yo este año

las primeras se realizan como sabe cuando se produce un incidente que reclama actuar mientras que las programadas evalúan de forma pormenorizada todos los aspectos medioambientales incluidos en la autorización además cada año se revisan las conclusiones del programa de vigilancia ambiental que debe presentar la empresa como así se ha hecho con los datos referidos a dos mil diecisiete

que pretende mejorar la labor de prevención y control integrados de la contaminación de determinadas empresas entre las que se encuentra esta

de que a finales de septiembre se ha procedido a actualizar la autorización ambiental integrada de smurfit que databa de dos mil ocho

papel y cartón que es a lo que se dedica esta empresa y así se imponen nuevos valores límites más reducidos en parámetros como partículas

o dióxido de azufre lo que rebajará la incidencia de la activad

y además se ha solicitado a la empresa la presentación de un informe único sobre suelos y aguas subterráneas

actualizada autorización ambiental integrada tiene una mención especial la existencia de un depósito antiguo de carbonato cálcico que es smurfit heredó

de la papelera se desconoce la fecha del vertido pero nos consta que la empresa dejó de usarlo

de vertederos concretamente en la revisión de la autorización se imponen medidas para asegurar los taludes de este depósito y el tratamiento de los lixiviados que se generan para evitar que afecten

y a las aguas subterráneas todas estas actuaciones

pero cuando se producen infracciones también sancionamos como corresponde y no solo por la vía de la autorización ambiental como se hizo el veintiséis de febrero del diecisiete a raíz de un expediente incoado a la empresa por motivos distintos a los lixiviados también en su caso por estos

pero también existe un control sobre las aguas residuales que se generan en la planta que deben de cumplir las condiciones fijadas

para su vertido al colector del consorcio de aguas bilbao bizkaia pues bien

tuvo conocimiento el día veinticuatro de abril a raíz de la denuncia de un particular de un vertido no autorizado al dominio público hidráulico procedente de terrenos de la empresa y ese mismo día

el servicio de inspección de ura acudió al lugar señalado y comprobó

del ibaizabal como causa del vertido se identificó el depósito

indicado este acumulo ya dio problemas en el año dos mil trece a raíz de los cuales la empresa realizó unos canales a su alrededor

desde donde se enviaban a su depuradora sin embargo se comprobó que a día de hoy esa solución no estaba cumpliendo su cometido

vertidos al cauce por eso el veintisiete de abril se envió desde ura

para que de manera inmediata corrigiera esa situación y que en el plazo de cinco días hábiles comunicase las medidas adoptadas el nueve de mayo

que indicaba que a raíz del requerimiento y leo textualmente con carácter regular y periódicos se vienen realizando por personal designado debidamente cualificado

y envío a la depuradora añade además

a la par que se dispuso una frecuencia diaria de las inspecciones

adicionalmente se están revisando los canales de drenaje para asegurar que no haya obstrucciones o filtraciones en ellos sin embargo en un nuevo informe del servicio de inspección de ura el dieciocho de mayo

dieciséis y diecisiete de mayo se han comprobado nuevamente que continua la contaminación del río por varios puntos además se toma una muestra de lixiviado que entre otros datos relevantes

de doce coma veintitrés y sólidos en su expresión de una concentración de doscientos cincuenta y ocho miligramos seños otero la analítica

la tengo aquí completa con doce parámetros si hubiese pedido la hubiese tenido

en consecuencia y a vista de que las sanciones adoptadas por la empresa no parecen haber resultado efectivas

dieciocho de mayo se nos remite de nuevo un requerimiento para que elimine ese vertido contaminante

o en su caso informe de las soluciones que plantea y con qué plazos de ejecución el veintinueve de mayo

para evaluar la situación actual y proponer acciones a realizar y anuncia que en cuanto siga enviando lixiviados al cauce

con un camión cisterna con una frecuencia mayor no obstante un nuevo informe de ura recoge que el dos de julio las visitas realizadas por inspectores entre los días veintiuno de mayo y veintinueve de junio en las que se comprueba que la situación se mantiene

y que llegan al río en al menos doce puntos distintos del cauce

dado que las medidas no han sido capaces de detener el vertido

el veintiuno de junio la dirección de gestión del dominio público hidráulico de ura propuso

por la comisión de una infracción prevista en la vía de aguas vertido no autorizado

el dos de julio de dos mil dieciocho al tiempo que se le requirió una vez más la adopción de medidas definitivas

causada como ve señor otero

no solamente aquí sino en los videos en los que usted también se promociona y actúa

está actuando además desde un primer momento desde el primer día que recibe la denuncia

en última instancia que perseguimos es un objetivo de garantizar que se eliminen esos vertidos

de cara al futuro teniendo en cuenta de que estamos hablando de un problema muy viejo

y cómo estaban en general los ríos en euskadi y efectivamente

la situación de lo que teníamos en los ríos en euskadi pero sin duda es algo que tenemos que cuidar y mantener no solamente con presupuestos y sino con vigilancia y control para que

de una cosa de que usted reconozca que tenemos un problema gordo

que ura ha estado dando vueltas por ahí que hay doce puntos de vertido

que los niveles de las analíticas son alarmantes yo me alegro de que existan las analíticas pero claro usted me dice

y eso es la demostración de que el sistema funciona y para mí es le voy a decir no sé si lo contrario pero yo la foto que le he enseñado la última foto que le he enseñado es de ayer

de seis meses y medio después de que ustedes tengan conocimiento creo que usted no tiene los mimbres para salir aquí ufano

cuando yo lo que le estoy diciendo es que tengo fotos y muestras de antes de ayer que están demostrando que el problema de contaminación lo seguimos teniendo igual

por lo tanto no sé cuál es el motivo de su alegría en este punto y usted

daba once coma cuatro de ph y usted me está diciendo que es doce coma veintitrés y me está hablando

que es todavía peor el valor es más alcalino

de carbonato cálcico y efectivamente

yo creo que tenemos un problema mayor que no es solo carbonato cálcico lo que estaba ahí derramado porque yo creo que las ortofotos lo pueden ver claramente y yo digo

de ese vertido que ha sido continuado durante años que está

y ustedes después de todos estos meses lo que me dice es

todo lo que ha hecho este gobierno es que han puesto una infracción administrativa oiga usted esta empresa en los años ochenta y nueve noventa cuando estaba a punto de poner la depuradora en marcha cuando se supone que ya había entrado la ley y tenía la depuradora en marcha fue denunciada porque estuvo

mucho tiempo vamos a dejarlo ahí tirando

al río sin depurar y fue condenada por ello hay una sentencia del año dos mil seis

condena a los responsables que no voy a decir su nombre como autores responsables de un delito continuado contra el medio ambiente

etcétera etcétera es decir entiendo que esto no tiene solamente una deriva administrativa hemos discutido mucho en este parlamento

medioambientales dónde está la cooperación entre departamentos

qué medidas ha tomado la ertzaintza porque y es una pena que no esté joseba egibar

que quien está investigando el caso es la guardia civil y no la hemos llamado nosotros cómo me puede decir que este gobierno

es un delito medioambiental estar hablando de infracciones administrativas

seguimos teniendo el mismo problema no tenemos medios como gobierno para poder ahí detener

vertido que está que sabemos dónde está lo tenemos localizado y la empresa tendrá una responsabilidad pero tenemos una situación de emergencia con respecto al río ibaizabal usted me dice que no tenemos manera de solucionar esto

una última reflexión yo le dije antes de ayer le critiqué en los presupuestos

el consejero de vivienda que el de medio ambiente y también criticamos

de publicidad y usted me dijo no no es que nosotros utilizamos la publicidad para

pues yo creo que había que empezar a pensar en serio que uno de los objetivos de esa publicidad tenía que ser que la ciudadanía supiera y fuera consciente

de las actuaciones que están haciendo ustedes porque no vale con ir el veintidós de mayo

a recoger mierda precisamente en el río ibaizabal en iurreta y de esto

gracias señora presidenta señor otero yo no

ningún motivo de alegría ni nada de esto he podido sonreír en un momento dado en el escaño o incluso aquí porque me ha traído usted unos botes así como si me descubriera américa y tenía la analítica en el bolsillo y por qué no se ha enseñado

tenga ningún motivo de alegría ni que me esté aquí rebozando

yo creo que usted sabe señor otero que este problema es un problema

como es el caso no se solucionan de la noche a la mañana y tampoco se solucionan haciendo un vídeo aunque le reconozco que lo he visto y sale usted muy bien no va a ganar el óscar pero sale usted muy bien en el vídeo

muy bien pero lo cierto es que antes que usted acudiera a las orillas del ibaizabal para grabar ese vídeo entre otras cosas los inspectores de ura ya habían estado ahí y

habían estado analizando las aguas habían estado

y tanto ura como la dirección de administración ambiental llevan bastante tiempo trabajando en este asunto como le he comentado en mi intervención anterior y hemos seguido trabajando con posterioridad no acaba el trabajo con la intervención que he tenido en una primera instancia

con una propuesta de actuación el plan propuesto por la empresa

consistía en mejorar el drenaje y construir junto al cauce un murete que contenga las filtraciones y permita bombearlas para su depuración

realizar un desbroce de la zona para ubicar los puntos de filtración sin embargo tras analizar la propuesta el informe técnico de ura va a ser denegatorio

debe abordarse a una distancia mínima de cauce de cinco metros

además el diecisiete de octubre se trasladó a smurfit el acuerdo de incoación de expediente sancionar en base a las infracciones cometidas y lo que le quiero decir es que

la conclusión es que el departamento no ha mirado en ningún momento para otro lado estamos ahí tanto la viceconsejería de medio ambiente como ura

y se está trabajando con rigor para proteger el medio ambiente y a la ciudadanía

que las soluciones tardan en aplicarse claro a mí también me gustaría poder adoptar medidas con mayor rapidez pero los procedimientos son los que son

tanto para sancionar como para encontrar las soluciones técnicas idóneas

la empresa que es la responsable de la contaminación por más que su origen sea un origen heredado nuestro departamento va a seguir poniendo todo el empeño en que cese este vertido de lixiviados al ibaizabal y que además la solución sea una solución que ofrezca garantías porque es nuestra obligación

una doble dirección desde ura y desde la viceconsejería de medio ambiente

debe incluir un informe sobre protección de suelo el trato que recibe esta empresa por parte de nuestro departamento es el mismo que se le da a cualquiera otra

de exigencia ambiental cuando hay incumplimiento o infracciones se actúa con forme

con motivo de los problemas de olores atribuidos a esta empresa que afectaron a iurreta y a durango se les sancionó por dos infracciones y se le exigieron medidas correctoras que parece que están funcionando y en este mismo sentido

y va a poner todo su empeño en que se resuelvan satisfactoriamente

es posible que cueste algo más de tiempo que la afirmación de su video pero le garantizo que no vamos a
parar hasta lograr el objetivo muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabigarren puntua

buenos días a todos hoy quiero hablar señor azpiazu de la ley dos barra dos mil siete que es la que

a la financiación de los presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi que como tiene un nombre muy complejo muy largo siempre le hemos llamado la ley de aportaciones y así nos entendemos todos rápidamente y me siento legítimo para ello señor azpiazu porque

como ciudadano de esta comunidad pago aquí mis impuestos y a mí me parecen interesantes saber qué parte de los impuestos que yo pago va a cada uno de los distintos niveles de la administración para recibir

nos prestan a todos los ciudadanos y como parlamentario lógicamente pues me interesa este asunto pues porque estamos en una situación un poco de prórroga un poco una situación un tanto

dos mil once y me refiero a usted cuando podría haberlo hecho a otro miembro del gobierno porque históricamente

los que se han sentido legitimados para responder a todas las interpelaciones y preguntas que se han hecho a este respecto en esta cámara y porque además usted ha sumido el compromiso en el calendario legislativo de traer el proyecto de ley

a esta cámara durante el dos mil dieciocho y no lo ha hecho todavía los hechos son muy sencillos

no puede tener una vigencia indefinida porque la situación de los distintos niveles de la administración las competencias que asumen

la evolución económica de los tres territorios puede ser diferente y eso también tiene su

tenía prevista una vigencia ordinaria desde dos mil siete hasta dos mil once y eso ya terminó hace mucho tiempo para el caso de que no se llegara a acuerdo con la nueva ley se permitió o

terminó hace mucho tiempo la excusa que se daba en aquel momento que

el señor gatzagaetxebarria ha dado en esta tribuna en varias ocasiones era simplemente que no no se podría hablar de la reforma de la ley de aportaciones en tanto en cuando

las negociaciones del cupo con el gobierno de españa desde nuestro grupo siempre nos parecía

ya no vale posteriormente se puso encima de la mesa que era necesario en euskadi una ley municipal y había que esperar a que esa ley estuviera aprobada para poder hincarle el diente

es más con esa ley nació una nueva excusa había que esperar

que era necesario en el plazo de un año elaborar para poder ver cuál era la situación de la financiación de cada una de las competencias de los tres niveles de la administración

aquí se han tomado ustedes un tiempo bastante largo si había un plazo de doce meses se han tomado veintiséis en elaborar el informe ya nos lo

y hace escasos días se presentó en esta cámara y yo le agradezco a usted que no tuviera que pasar el mal trago de traer ese informe a explicarlo a la cámara porque el informe yo creo que no cumple las expectativas que todos teníamos ni siquiera

tremendamente los plazos se salta la ley a la torera pero ni siquiera cumple el objeto de la misma que era

claro y sincero de cuáles eran las competencias cómo se estaban financiando y sobre todo dar los argumentos para abordar la reforma de la ley de aportaciones

insisto estamos en una prórroga extraordinaria desde el año dos mil doce nos estamos saltando la propia ley de instituciones de euskadi

pero es que también nos estamos saltando la palabra de su gobierno y un compromiso que personalmente usted

reforma de la ley de aportaciones con lo cual tenemos unos hechos que no están de acuerdo con la ley unas leyes que están siendo pisoteadas por la voluntad del gobierno de no

un nuevo proyecto de ley y ese es el motivo de mi interpelación de hoy que más que

dirigida señor azpiazu a requerirle o a preguntarle sobre cómo están las cosas es en el otro sentido de la palabra interpelación es prácticamente una súplica

porque antes tuvieron también un problema y es que dentro del consejo vasco de finanzas estaban representados

porque gobernaban cada una de las tres diputaciones de los tres territorios históricos pero en este momento ese gobierno es monocolor es su partido señor azpiazu el que está al frente de los departamentos de hacienda de esas tres diputaciones y por lo tanto se entiende o se

llegar a un acuerdo entre los compañeros de partido que no entre una serie de fuerzas políticas con intereses antagónicos o intereses diferentes

a un acuerdo en algo que es importante para todos parece ser según nos han dicho en el informe que usted

nos envió a la cámara que todas las instituciones están suficientemente bien financiadas por lo que

que no va a haber una ley de aportaciones puesto que todo está correcto y todo está bien hecho y así no tenemos ningún problema lo que yo quiero saber es se está haciendo algo desde el gobierno para traer aquí la reforma de la ley de aportaciones qué pasos se han dado en el último consejo vasco de finanzas

cómo van esos trabajos porque yo no sé qué es lo que ocurre dentro de ese consejo pero sí sé qué es lo que dicen los distintos diputados generales de su partido cuando tienen que hablar del reparto de la financiación porque hay dos diputados generales que se quejan de que están pagando los deberes de un tercero del territorio más grande y del que más volumen económico tiene por lo visto cuando están fuera del consejo vasco de finanzas

pero cuando están dentro parece ser que o su peso específico es muy pequeño o realmente no se discute este asunto por no hablar de eudel en mi vida profesional me ha tocado años atrás ver la financiación

la posición de los ayuntamientos era de clara queja no había financiación desde las diputaciones forales a los ayuntamientos suficiente para atender todas

y no era una posición única de los ayuntamientos alaveses eudel

gracias a la aprobación de la ley municipal están incumpliendo al no traer aquí ese proyecto de ley además con la regulación que nos hemos dado nosotros mismos es una labor que no pueden hacer los grupos parlamentarios carecemos de iniciativa legislativa nosotros no podemos proponer

la única iniciativa la corresponde al gobierno y por eso le pregunto

haciendo qué es lo que está pasando en ese consejo vasco de finanzas y por qué ese proyecto de ley no se está tramitando ya en esta cámara muchas gracias eskerrik asko

entiendo su preocupación y espero aclarar las cuestiones que a usted le preocupan cuando usted decía que el consejero anterior decía que era una disculpa usted decía que era una disculpa que había que llegar a un acuerdo en relación del tema del cupo en madrid yo sinceramente pienso

antes de volver a redistribuir a través de una ley los recursos internamente pienso y eso es verdad que se ha cumplido con lo cual esa excusa ya no hay

no es ninguna excusa lo de la ley municipal yo creo la propia lile actualmente establecía que había que hacer primero un análisis para ver efectivamente si de ese análisis se desprendían algunos cambios o no

integrantes del consejo vasco de finanzas públicas recibieron el documento de análisis general de las competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales

conocido como el informe lile al que usted hace referencia en esta interpelación

del mismo en dicho análisis se concluye que si bien la capacidad financiera de cada una de las instituciones locales de la comunidad autónoma de euskadi es muy diversa

para el desarrollo de sus competencias asimismo

atienden de manera adecuada las competencias propias de cada uno de ellos estando

reflejada de manera correcta este análisis ha sido desarrollado por un grupo de trabajo formado por representantes del gobierno vasco de las tres diputaciones forales y de eudel se trata de un análisis de naturaleza general tanto

y de las interrelaciones de los niveles institucionales y del sistema de financiación de cada nivel institucional como de la adecuación distribución del gasto público en función de las competencias atribuidas el estudio ofrece una visión completa del gasto

institucionales con un diagnóstico basado en los datos del ejercicio dos mil quince si bien las conclusiones obtenidas resultan hoy igualmente aplicables

que deberán ser estimadas por el consejo vasco de finanzas de cara a tenerse en cuenta o no en la nueva metodología de las aportaciones

ustedes conocen además como ha comentado el contenido del informe con detalle porque la viceconsejera de hacienda lo presentó en este parlamento

concluir este año este es nuestro compromiso concluir este año dieciocho

de aportaciones los trabajos técnicos para la renovación de la ley de aportaciones

y puedo decirle que van por el buen camino se está trabajando intensamente el resto de las cuestiones sujetos a acuerdo van avanzando también por lo que esperamos que las instituciones representadas en el consejo vasco de finanzas públicas acordemos la nueva metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las diputaciones forales a la financiación de los presupuestos de la comunidad autónoma del país vasco antes de que finalice este año dieciocho dando como le decía cumplimiento

por este consejo en octubre el compromiso de las instituciones es la negociación y el acuerdo de una metodología ese es nuestro propósito en relación a esta ley luego está el acuerdo que deberá ser elevado al consejo de gobierno para su remisión como proyecto de ley de lectura única

somos conscientes de que nos falta un parlamentario o una parlamentaria o de un grupo político aunque trabajemos para tener un consenso lo más

o con su grupo parlamentario no es una ley cualquiera

de un alto grado de consenso institucional y político porque nos hallamos ante un debate que concierne a los tres niveles institucionales del país y además es una ley que ha de aprobarse en el parlamento vasco debemos conjugar

de las diversas políticas públicas y las legítimas aspiraciones de cada administración de contar con la mejor financiación para sufragar sus servicios públicos

se trata por tanto de elaborar y aprobar una ley con cuyas conclusiones todos cómodos e identificados una ley que a la vez que tenga en cuenta las características socioeconómicas que también ha hecho usted referencia en su intervención

proporciona asimismo un horizonte de certidumbre y estabilidad al conjunto de nuestro sistema institucional una ley que debe continuar basándose

son las dos caras de la misma moneda neutralidad y suficiencia financiera

eventuales modificaciones que hayan de incorporarse a la nueva normativa y suficiencia financiera de modo y manera que todas y cada una de las instituciones vascas

para el ejercicio de nuestras respectivas competencias y el desarrollo de nuestras políticas públicas repito neutralidad y suficiencia financiera y reitero de nuevo el compromiso firme de las instituciones vascas

de finanzas públicas de presentar un primer borrador de acuerdo y una metodología de la ley de aportaciones este mismo año

señor azpiazu el compromiso que usted adquirió no era

aprobara un primer borrador de acuerdo entre ustedes para luego someterlo a los trámites necesarios el compromiso era traer un proyecto de ley en dos mil dieciocho

y no se está tramitando usted nos dice que es necesario un consenso importante dentro de esta cámara y que les falta

las conversaciones con los distintos grupos de la oposición son tres nada más

a mí lo que me parece señora azpiazu es que el problema

yo creo que aquí el problema no está en llegar a concitar los acuerdos necesarios de la cámara para que salga adelante la votación ustedes lo que tienen es un lio interno de partido

dentro del consejo vasco de finanzas y usted dice que siguen trabajando y siguen con este asunto pues yo creo que no yo no creo ni siquiera que hayan iniciado una discusión seria usted no me lo ha reconocido en ese sentido el informe lile es de junio

se ha llegado a algún acuerdo en ese consejo vasco de finanzas hay unos trabajos ya hechos

antes de que acaben el dieciocho estamos ya en noviembre señor azpiazu

igual está dejando de lado este asunto tan importante y es que el problema señor azpiazu es que ya se ha saltado tanto los plazos que tampoco pasaría nada por un pequeño retraso más pero es que en dos mil diecinueve

y en esas elecciones forales posiblemente los ciudadanos cambien el color de algunas de las instituciones que se sientan en el consejo vasco de finanzas pueden cambiar los pesos

de las tres diputaciones forales o de al menos alguna de esas diputaciones forales y el consenso político igual no es tan sencillo como debiera serlo ahora

ustedes se están saltando la ley o las leyes y desde luego su palabra y su compromiso el calendario legislativo aprobado por su gobierno que nos presentaron aquí con tanto orgullo se incumple sistemáticamente por un

dentro del partido nacionalista vasco ese es el problema el equilibrio de poderes internos que tiene entre los tres territorios históricos y los municipios dentro del partido nacionalista vasco que eso se está reflejando en el consejo vasco de finanzas y de ahí vienen todos los incumplimientos legales

que un lio interno de partido un juego de poderes del partido nacionalista vasco haga que el gobierno incumpla sus compromisos incumpla su palabra y se salte a la torera todos los plazos establecidos por las leyes vigentes y aprobadas

de este problema yo lo que sí sé es que estábamos trabajando desde hace un montón de tiempo entre el conjunto de las instituciones que básicamente somos del partido nacionalista vasco efectivamente pero aunque

estamos trabajando en esta cuestión que nos preocupa y nos ocupa pero desde luego preferimos hacerlo con cierta calma que no hacerlo con una premura y aprobar una ley que luego tengamos problemas en el futuro dice que no le hemos llamado y ya les llamaremos estamos trabajando

es que haya un proyecto aprobado en el consejo vasco de finanzas y si hay un proyecto este año aprobado por el consejo vasco de finanzas se lo trasladaremos y les explicaremos a ustedes el contenido

acordado entre las instituciones y después buscar ese consenso entre los grupos parlamentarios yo creo que ahí efectivamente usted ha dicho al principio no es una ley a la

habrá que apoyarla o no pero desde luego habrá que apoyarla o no una propuesta que hagan el conjunto de las instituciones que son las responsables

de esa ley no estamos en ninguna situación irregular estamos en prórroga la prórroga está perfectamente prevista en la ley de aportaciones la prórroga

raros en el sentido de que esta ley no funciona no no claro que he leído algunos artículos en la prensa de que saben que hay una serie de diferencias en un territorio o en otro

de cuestiones si es posible y yo creo que sí yo creo que sí lo estamos haciendo desde luego con voluntad política para que esto sea así usted ahora se acuerda que de hecho en menos de un mes después de mi nombramiento

a una ley faltaba además de hacer entre otras cuestiones el estudio

que era preceptivo como le comentaba y lo hice desde el convencimiento que es mejor tardar más para hacer una buena ley

el que nos sintamos a gusto y comprometidas todas las instituciones

a disgusto e incomodos y lo volvería a hacer volvería a retrasar un plazo con tal de llegar a un acuerdo favorable

creo que es mejor dedicar el tiempo necesario para hacer bien las cosas que no hacerlas rápido y mal

porque nos hallamos ante un debate que concierne a los tres niveles

implíquese implíquese como decía que conjugar el complicado equilibrio entre la cobertura financiera de las diversas políticas públicas

de contar con la mejor financiación para sufragar los servicios que cada una de ellas

se trata por tanto de elaborar y aprobar una ley con cuyas conclusiones todos nos sintamos cómodos e identificados una ley que a la vez que tenga en cuenta las características socioeconómicas

proporcione un horizonte de certidumbre y estabilidad al conjunto de nuestro sistema institucional y para terminar me gustaría tranquilizarle

a insistir en el compromiso que ya trasladamos tras el consejo vasco de finanzas de octubre que es concluir

un borrador al menos de la metodología de la nueva ley de aportaciones

especialmente del señor erkoreka no me ha quedado más remedio que mantenerla voy a hacer un ejercicio

digamos de futurible y vamos a suponer

proyecto de ley de presupuestos que usted nos ha traído se aprueba

uno de enero entre las previsiones que contiene el artículo diecinueve punto uno está la subida de los funcionarios del dos coma veinticinco

luego tiene una disposición adicional sexta la rgi el dos coma veinticinco y luego una disposición final modificación de la ley de retribución del altos cargos donde

altos cargos personal eventual del gobierno etcétera no interinos ni laborales ni cosas de estas como nos explicó el señor erkoreka que es que era una cosa de justicia para ellos pero es que ellos aquí en estos artículos no aparecen ninguno entonces mi pregunta es muy simple

los funcionarios no van a tener una subida del dos coma veinticinco y usted lo sabe como yo lo sé

el incremento que queramos por qué porque la legislación básica que son la ley de presupuestos de este año vigente

entonces mi pregunta es muy simple yo ya sé que los sueldos del gobierno los aprueba esta cámara sin esas limitaciones

que esta cámara ha aprobado estos presupuestos que usted nos ha traído doy por hecho que usted no va a poder subir el sueldo a los funcionarios el dos coma veinticinco como no lo pudo hacer el uno de enero del año pasado para esta subida de este año y hubo que esperar a que los presupuestos del estado se aprobaran con esa subida den uno coma cinco

de hecho el sueldo de los funcionarios los del gobierno sí se van a incrementar o no se van a incrementar porque eso no nos quedó claro además de

completamente decía se mantendrá por el gobierno el incremento de salarios

consistentes en la percepción de una cantidad por cada trienio previsto en el proyecto de presupuestos del diecinueve aunque no se incrementen los sueldos de los funcionarios en la cuantía prevista

no me aclaro mucho pero hoy me la has intentado explicar y no sé si del todo pero creo que algo intuyo y le voy a intentar explicar el martes yo pensaba que en mi comparecencia

en la comisión de hacienda y presupuestos que precisamente usted preside y también creo que quedó claro cuando el señor erkoreka explicó después pero voy a explicarlo otra vez hay dos cuestiones en su pregunta dos cuestiones que están en el proyecto

las dos pero que son independientes una es la subida del salario para el personal que trabaja en la administración sean funcionarios eventuales o altos cargos

y esta se dará para todas las personas desde el uno de enero en el caso de que se apruebe la ley de presupuestos del año que viene y segundo se contempla en el proyecto de ley una disposición a la que ha hecho referencia que modifica la ley de altos cargos con el fin de reconocer

o simplemente no son funcionarios este reconocimiento lo que pretende señor damborenea es corregir una manifiesta desigualdad que se está produciendo básicamente entre los que son funcionarios y no lo son

al servicio de la administración de la comunidad autónoma de euskadi

era bastante clara y se entendía no hablábamos de interinos ni de nada hablábamos de gobierno altos cargos y personal eventual de ese gobierno

que los altos cargos el gobierno sus retribuciones se fijan en la ley de retribución de altos cargos que dice que es este parlamento el que lo fija y de hecho

y no está sujeto a las limitaciones de la legislación básica de los funcionarios entonces por eso nuestra pregunta es la siguiente usted prevé

pero usted y yo sabemos que el uno de enero no va a poder subir el dos coma veinticinco por qué porque no tienen la ley de presupuestos del estado que modifique la vigente

segundo ya que me habla usted de los trienios tampoco nos ha quedado claro si es con efectos retroactivos o no porque eso no viene en el texto que ustedes han mandado ustedes lo único que dicen es que se modifica la ley de retribución de altos cargos

y devengarán trienios punto lo que no

en el entero en el conjunto los funcionarios tienen

respecto a los que no son funcionarios o respecto a los que no somos funcionarios pero eso ocurre en todas las administraciones

los no funcionarios devenguen trienios es una novedad dentro de lo que son las administraciones públicas no del país vasco del país vasco y del resto de españa

y por eso eskerrik asko damborenea jauna denbora agortu zaizu la pregunta es simple sí o no

señor damborenea no son trienios son antigüedad le vuelvo a reiterar que el gobierno si aprueba los presupuestos

desde el primer mes del año debemos cumplir nuestra ley

los salarios el primer mes de este incremento del dos coma veinticinco que usted sin duda conoce

sino de lo que este gobierno ha considerado adecuado en función también de los acuerdos que en su día

con los sindicatos de la función pública en el estado y con la creencia de que serán

en todo caso entendemos que tenemos el título jurídico suficiente para ello y con las prevenciones necesarias para su viabilidad real

y eso también está en sus manos en lo referente al reconocimiento de la antigüedad a los altos cargos que hoy en día

para paliar insisto un desequilibrio y corregir yo lo que considero una manifiesta desigualdad como sabe señor damborenea los altos cargos que tienen plaza de funcionario que es mi caso

y como imagino que también sabrá que sus importes

ya que los altos cargos funcionarios no cobramos por productividad

las dos cuestiones que a usted le preocupan se podrán solventar

ninguna de ellas espero haberle aclarado las dudas señor damborenea al respecto e insisto el que haya unos presupuestos el próximo año también depende de usted eskerrik asko

discurso cada centro coordinador territorial mantiene una relación especial

la manera de actuar y los protocolos también son diferentes en muchos casos el protocolo para la donación de órganos es diferente en gipuzkoa

por territorio exactamente lo mismo que con el código ictus en el caso de gipuzkoa

el personal médico que está en formación rota en ambulancias y centro coordinadores y tienen que conocer a sus pacientes

de conocer a sus pacientes porque además creemos que eso supone un plus en la atención las personas que trabajan en esos centros

con la particularidad que eso implica conocen

la singularidad de cada municipio de sus calles hagamos un ejercicio práctico señor entra una llamada en el centro coordinador de bizkaia he llegado a casa y mi marido

dónde vive usted en la calle navarra seguro que lo primero que nos viene a la cabeza es la calle navarra en bilbao entra esa misma llamada

en la calle navarra de qué municipio irun tolosa

ahora imaginemos que los centros estén unificados y entre una llamada desde gipuzkoa atendida por un trabajador o trabajadora de araba cree usted

en su turno pero insistimos si lo que pretenden es unificar los tres

en uno solo deberán de explicarnos muy bien las bondades de su planificación si la tienen porque de momento nosotras no encontramos ninguna así que explíquenos se así lo considera en qué va a mejorar la atención

de ictus a los infartados con la unificación de los tres centros cuéntenos como esa unificación va a ayudar a cualquier persona a materializar su deseo de donar órganos por ejemplo

explíquenos si así lo cree conveniente en qué va a ayudar que los trabajadores y trabajadoras se tengan que desplazar

de lo que lo hacen ahora dígannos si con la decisión que han tomado y han puesto encima de la mesa creen que ante situaciones de emergencia vitales en muchos casos se va a prestar

osakidetza no tiene ninguna decisión en firme tomada con respecto a la unificación o no de los centros coordinares de emergencias

a día de hoy es realizar un análisis riguroso que nos ayude a tomar la decisión más adecuada siempre desde la perspectiva de eficacia eficiencia y calidad del servicio que deben presidir la gestión del sistema sanitario público de euskadi y además estamos convencidos de que el debate fundamental

tres o más el debate fundamental es si necesitamos un modelo de atención integral y por lo tanto en ese debate

tome la decisión junto con el departamento de seguridad eso creo que es la principal clave yo soy plenamente consciente de la importancia del servicio de emergencias

en el ya lejano mil novecientos ochenta y tres

de los recursos en situaciones de emergencias pero me va a permitir remarcar los centros coordinadores se crearon

y se apostó por un modelo de coordinación de emergencias en cada territorio histórico de acuerdo a la situación y recursos humanos y tecnológicos

no creo que nadie de manera racional pueda cuestionar que treinta y cinco años después y con la tecnología y los recursos disponibles hoy no unifiquemos

sobre el modelo de coordinación de emergencias que necesitamos para la euskadi del siglo veintiuno o sobre qué mejoras necesitamos para los próximos treinta y cinco años cuántas organizaciones y servicios conoce usted que no han realizado ninguna modificación sustancial

el ciento doce un teléfono fácil de recordar para todas las llamadas de socorro con independencia de la naturaleza de la emergencia este sistema ha permitido sin duda alguna

y ordenada coordinando los diferentes recursos con independencia de su origen

quiero aprovechar la pregunta para agradecer y felicitar a los diversos equipos de intervención que trabajan en este ámbito por la gran labor que realizan y me refiero

a las policías municipales a los bomberos a la cruz roja a la dya a la federación vasca de montañismo y a los diversos grupos de voluntarios que colaboran en la atención de emergencias de euskadi cada uno de estos estamentos

una labor y tiene unas funciones establecidas y creo sinceramente que la coordinación y cooperación en este ámbito ha sido un verdadero logro y es lo que debemos garantizar

en sustitución del antiguo servicio de atención urgente ha dicho usted por qué estaba compuesta por los centros coordinadores por los equipos de emergencias y por el transporte sanitario hasta la década de los noventa los centros de coordinación de emergencias sanitarias

fue entonces en la búsqueda de mayor eficacia y eficiencia en el conjunto del sistema de emergencias cuando se tomó la decisión de integrar los centros de coordinación sanitarios en las instalaciones de sos deiak en los tres territorios

y se adoptó un modelo de centro coordinador conjunto entre los recursos de seguridad entonces interior

y este modelo de centro coordinador integral es lo que en mi humilde opinión es el principal factor de éxito

el mejor servicio de coordinación de emergencias los cambios no solo han afectado la ubicación sino también a las diferentes plataformas informáticas hasta finalmente la unificación en una plataforma tecnológica única que da soporte a lo que hoy conocemos

mensajería etcétera y permite compartir información prácticamente de manera instantánea entre todas las agencias que intervienen

bomberos osakidetza etcétera todo esto

ha permitido a dar respuesta a la demanda de este servicio con criterios de eficacia y calidad y la actividad que realizan es como decía en mi primera intervención muy importante solamente el año pasado

además hay que tener en cuenta la importancia de la respuesta rápida y diligente

que desde su creación se ubicó en el centro de coordinador de emergencias de bizkaia por esto al escuchar su interpelación

me ha preocupado el que pensemos en anteponer los derechos laborales de los trabajadores que los tienen

terriblemente sensibles al modelo de coordinación que necesitamos porque lo fundamental es el modelo de coordinación si tiene que haber un centro

o si tenemos que mantener los tres es un debate importante muy importante pero lo principal

una coordinación integral no para haber frente a la movilización de ambulancias que también y no digo que no sea muy importante

importante con múltiples víctimas en cualquier momento tenemos un modelo de emergencias de coordinación conjunta entre los recursos de los departamentos de seguridad y salud después de décadas de trabajo conjunto estamos obligados a explicar a la sociedad cuáles son los motivos para cambiar el modelo y si debe prevalecer en mi opinión sí

versus el número de centros y desde luego en mi opinión versus las condiciones laborales y también hay que valorar rigurosamente si la coordinación de emergencias en euskadi

en el siglo veintiuno hacen falta tres centros coordinadores o uno esté en gipuzkoa en álava

en nuestro entorno y en las sociedades punteras e innovadoras

un infarto es igual en bizkaia en álava y en gipuzkoa

en álava o en gipuzkoa pese a que le hayan aconsejado así no hay ninguna diferencia en un país con dos millónes de habitantes y la prueba está en que madrid que triplica nuestra población

y no hay ningún problema con el código ictus parís tiene un centro coordinador

y en el código infarto nosotros tenemos un modelo de contratación donde no somos capaces de garantizar que la población viva al lado de su trabajo por lo tanto

como se da el caso algún trabajador que vive fuera de la comunidad y no cuestionamos la calidad del servicio que prestan y no creo que ninguno de los trabajadores

yo conozco un poco la orografía de gipuzkoa y me parece francamente importante pero no me atrevería yo a decir que la orografía de gernikaldea del área de bermeo

sea un factor diferencial no creo que esté ahí porque tecnológicamente está resuelto conozco un poco el modelo de trasplantes porque he sido coordinador de trasplantes del hospital de cruces

en asistolia es menor del quince por ciento y en cualquier caso

con un centro coordinador por lo tanto no está ahí la clave y luego todos los trabajadores de osakidetza quieren vivir al lado de su centro de trabajo

solo faltaría los de emergencias los del hospital donostia los del hua y los hospital de san eloy y yo también

pero no creo que ese sea el factor por el que tenemos que tomar decisiones por si en una

y vuelvo a decirlo creo que es absolutamente respetable los derechos laborales de los trabajadores vamos a contar con ellos le vuelvo a repetir que no hay ninguna

las suyas las del resto de grupos y también

gertatu dena eta hau nondik dator barne sailetik dator ha nombrado usted el departamento de la señora

enero de dos mil dieciocho grupo noticias

de gipuzkoa y araba en enero la señora beltrán de heredia ya nos estaba dando alguna pista

con qué intención eso no lo sabemos eso lo saben ustedes no hay planificación

planificación y si la hay la vigilaremos de cerca y como siempre intentaremos hacer aportaciones aunque no la tengan en cuenta dicen ustedes que hay un análisis riguroso dónde está dónde está ese análisis riguroso

un análisis y que no haga falta una reflexión pero es que ustedes han tomado una decisión y ahora lo que han hecho es echarse atrás porque han visto la que se ha montado en su día sí hubo una planificación una planificación que se quedó en vía muerta por qué por la posibilidad de unificar los centros y por cambiar y reasignar y modificar los roles de trabajadores y trabajadoras que no señor darpón que no que esto es vox populi entre los trabajadores

altos cargos de su departamento que de manera oficiosa han trasladado a los trabajadores y trabajadoras la intención de la unificación

trasladado admitan que se han equivocado que no pasa nada y que lo van a intentar reconducir pero no nos intente vender una película que no es

zer egin behar den anabasa hau zuzentzeko pero es que usted en lugar de admitir

los trabajadores y las trabajadoras o sea nosotros no anteponemos

lo que he dicho es que es un factor más y le he enumerado unos cuantos y ese también hay que tener en cuenta

no no lo han hecho por gusto no el gerente de emergencias el señor unanue que no me ha dicho nada

porque se quería jubilar también se quería jubilar igual que la

se quería jubilar nada que ver con las denuncias por presunta violencia psicosocial se ha jubilado se da cuenta de lo que está ocurriendo estos últimos siete meses se da cuenta hoy vuelven a salir en la prensa otra vez dos veces

y no precisamente para vender un maravilloso plan dos veces es que ya no podemos más creo que hemos sido suficientemente pacientes con esto con lo otro con las ope se nos está acabando la paciencia

la paciencia y los ceses nombramientos está en sus manos usted es el consejero del gobierno cesa al consejo del gobierno nombra con esta interpelación

habrá una moción y el lunes nos veremos el lunes nos veremos porque vendrá a explicar las ope y estaremos con la mente abierta

como siempre pero una cosa le voy a decir nos está cargando de argumentos estamos teniendo cada vez más motivos más motivos para materializar

darle una clase de anatomía en respuesta a la pregunta porque usted ha pasado a la ope a salud pública al gerente de no sé qué

presente usted lo que quiera señora eva presente usted lo que quiera señora blanco lo que quiera y si no lo ha presentado por algo será no me cuente cuentos chinos no me cuente cuentos chinos mire no hay ningún caos

está en su grupo con la duda de si apoyan o no los presupuestos

no hay ningún proyecto de unificación va a haber un estudio va a haber un estudio y luego en la primera parte no me ha hablado

porque no hay ninguna dificultad con los infartos en un centro o en dos o en tres no hay ninguna dificultad con el ictus no hay ninguna dificultad con me está hablando usted de las condiciones laborales de las personas que trabajan en gipuzkoa

y si decidiéramos ponerlo en gipuzkoa que también me parecería igual de bien pues protestarían los de bizkaia y por este criterio le sobran a usted el consejero de salud porque lo que hay que hacer es precisamente nada

nada bien no es un problema de gasto es un problema de eficacia y es un problema de revisar un modelo que tiene treinta y cinco años y créamelo no hay ninguna decisión tomada para poner un solo centro no hay ninguna decisión tomada para que ese centro esté en bizkaia

y otro de respaldo hay que tomarla hay que tomarla porque lo que no tiene sentido

lo que tenemos sin reflexionar un modelo de hace treinta y cinco años bien el tema no es baladí

pueden tener importantes repercusiones por ello precisamente lo vamos a analizar en profundidad

de los siguientes ámbitos el impacto sobre la atención sanitaria de las emergencias en la sociedad vasca pensando pensando realmente lo importante que es si hay una catástrofe o hay un accidente con múltiples víctimas

que aunque usted no lo crea me preocupan más a mí que a usted porque son mi responsabilidad si fuera la suya igual otro gallo cantaría el impacto en la plataforma tecnológica que actualmente da soporte a la actividad de emergencias

para los equipos profesionales estos son los aspectos que se van a analizar en profundidad para tomar la decisión más conveniente para la sociedad vasca para nuestros profesionales y para el propio servicio de emergencias y luego reflexione usted un poco reflexione usted un poco

necesitamos tres o porque en bizkaia con un millón ciento y pico mil habitantes

y porque cataluña tiene uno y otro de respaldo madrid tiene uno y otro de respaldo paris tiene uno

créame que me halaga cuando dice que les colmo la paciencia porque es que mi objetivo jamás ha sido tenerles a su grupo contentos mi objetivo es trabajar para la sociedad vasca y que osakidetza siga funcionando

las cosas difíciles unidos a los acontecimientos de las últimas semanas hay que sumar las irregularidades de la ope de osakidetza dos mil dieciséis dos mil diecisiete

los últimos sucesos han sido los siguientes la dimisión del director de emergencias tras conocer el proyecto de unificación de los tres centros de coordinación de emergencias en los tres territorios y

y por cierto no sabemos cómo se va a implantar ese proyecto no sabemos el impacto que puede tener dicho proyecto en la calidad

de emergencias hombre yo sí me he quedado un tanto preocupada al oírle en la respuesta a mi antecesora la señora blanco

a la dimisión del director de emergencias que ha dimitido aparentemente y hay que relacionarlo con este proyecto o este anuncio de unificación de los centros de emergencias en uno solo

reflexión para establecer mejoras pero a la vez también nos han dicho

un cambio de modelo por lo tanto sí que nos gustaría aunque mi objeto de la interpelación es mucho más amplio y va mucho más al grano a propósito de todos los acontecimientos que están sucediendo en su departamento

que exigen entendemos una respuesta y toma de decisiones concretas en relación a esclarecimiento de hechos y en relación a la asunción

sí nos preocupa porque no sabemos si es una mejora manteniendo el modelo actual o supondría cambiar un modelo y qué impacto y en qué se concreta ese cambio de modelo que hasta ahora lo único que sabemos es que se ha concretado en la dimisión

director gerente del servicio de emergencias otro de los hechos que hemos conocido recientemente ha sido el del cese de la directora de salud pública y adicciones

o ponerse de manifiesto las denuncias por trabajadores de su servicio por violencia psicosocial desde hace cinco años la denuncia hay que señalar que fue interpuesta en el mes de junio y a pesar de que esta situación hay que decir que era conocida con anterioridad

no se ha hecho nada y no se tomó ninguna decisión y digo esto porque esta decisión parece que era conocida por la responsable de la dirección de régimen jurídico y servicios

durante los años dos mil catorce dos mil quince y dos mil dieciséis la señora múgica

y que en su momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto a nosotros nos gustaría saber por qué

no se tomó ninguna decisión al respecto y voy a la

consejero no desaparecen permanecen están ahí y nosotros volvemos a reiterar que necesitan ser resueltas y la resolución conlleva

si no señor consejero y se lo digo sinceramente y no me canso de reiterarlo corremos el riesgo de cerrar este apartado

apartado de las filtraciones de las ofertas públicas de empleo en la oferta pública de empleo dos mil dieciséis dos mil diecisiete

y digo esto sin perjuicio de las actuaciones que se puedan llevar a cabo por el ararteko por la fiscalía actuaciones que de hecho se están llevando a cabo

y que se pueden desarrollar y desde luego señor consejero

otras instancias para dar carpetazo definitivamente a este asunto porque ahí están las filtraciones

reconocidas y están en las conclusiones de los expedientes informativos

trabajos que se han realizado por parte del departamento y también a las conclusiones a las que obviamente hemos llegado los diferentes grupos especialmente los grupos de la oposición que hemos tenido ocasión de analizar toda esta información

más ambiciosas de la historia de osakidetza

con unas expectativas concretas con la intención un futuro asegurado por la que han trabajado mucho y que desde luego esas expectativas que tenían cuando conocieron el anuncio de esta ope y cuando se presentaron podemos decir que muchos de ellos los han visto frustradas y nosotros desde aquí nuevamente nos queremos

con todos ellos se ha procedido a la apertura de varios expedientes informativos primero uno luego tres luego cuatro

se realizaron los análisis psicométricos de la universidad se tomó la decisión por parte de los tribunales aunque sí como

tuteladas esas decisiones de la repetición de los exámenes con fecha once de julio por la dirección de recursos humanos

se habían abierto algunos expedientes disciplinarios a un vocal de pediatría en traumatología tampoco hemos entendido hasta la fecha la motivación de la apertura en este caso de un expediente

a esta especialidad y en relación a miembros del tribunal que tuvieron alguna reunión pero que no tuvo consecuencias directas en decisiones plasmadas

en sus resultados y por qué no se han abierto expedientes informativos en otras especialidades

quedan muchas dudas sobre este proceso de selección las conclusiones hablan claramente de indicios de irregularidades que se han detectado que se sabe dónde están

otra cuestión es de si de esas actuaciones irregulares señor consejero se desprende

pero eso obviamente señor consejero no le corresponde a usted dilucidarlo pero sí le corresponde dilucidar y actuar en otros ámbitos en los que usted tiene responsabilidad como le decía en los informes psicométricos no se descarta

hay hechos constatados aprobados las mejores notas están agrupados y a cierta distancia de los suspendidos los aprobados las mejores notas

con una posición de cercanía a ciertos centros hospitalarios los aprobados las mejores notas a distancia de los demás a mucha distancia

que han sido las personas que han realizado los exámenes y algunas de ellas

de los tribunales todavía señor consejero y vuelvo aquí a formular la pregunta no tenemos respuesta a la pregunta reiterada que le hacemos cada vez que tenemos oportunidad de hablar sobre esta cuestión de quién

al ivap no tenemos esa respuesta y creo que esa respuesta es clave para llegar de este asunto y voy finalizando señor consejero pero usted

la última comparecencia el pasado mes o la comparecencia del diecinueve de julio nos hablaba

textualmente de investigar aclarar tomar medidas para culminar el proceso con las máximas garantías

y haremos los esfuerzos en aclarar totalmente lo acaecido lo acaecido esto nos decía el señor consejero

afirmaciones que usted nos ha hecho en sede parlamentaria esto conlleva ineludiblemente

y hasta donde haya que llegar porque las irregularidades y las filtraciones

dos mil diecisiete no pueden cerrarse en falso

sobre un sistema valorado prestigiado y sobre el que además

hay una credibilidad por parte de los ciudadanos y un sistema precisamente bien valorado por el trabajo que día a día

sus profesionales en definitiva señor consejero algo no se está haciendo bien demasiados asuntos cuestionan y ponen en entredicho la gestión

y por lo tanto es necesario cambiar de rumbo y el cambio de rumbo

que es el máximo responsable por eso le hemos formulado esta interpelación señor consejero va a hacer alguna reflexión

se va a asumir ya de una vez por todas alguna responsabilidad besterik gabe

gestionar el departamento de salud del gobierno es sin duda una tarea compleja y de la máxima responsabilidad

antes y después de cada decisión y también de asumir la responsabilidad ante los sucesos y circunstancias que ocurren diariamente en el sistema sanitario de euskadi estoy convencido de que usted es consciente del tamaño y la complejidad del departamento de salud aun así le daré unas pinceladas para que podamos hacernos una idea de la tarea de la que hablamos

el treinta y dos coma dos del presupuesto total del gobierno vasco o si lo prefiere usted de un tercio

a través de su dirección general gestiona trece organizaciones sanitarias integradas

ciento cincuenta y tres centros de salud ciento sesenta consultorios además

centro vasco de salud de transfusión y tejidos humanos etcétera

y trabajadoras sin duda alguna cada día se toman muchas decisiones y todos los días hay algún problema y alguna novedad no en vano atendemos

personas todos los días del año es un departamento muy dinámico y sin duda alguna exigente

trabajamos cada día con el objetivo de seguir mejorando

la mayor parte de las preguntas que usted me ha hecho han sido contestadas en las diferentes comisiones donde precisamente no he sido cicatero a la hora de comparecer

en todos los grupos parlamentarios puesta en el ararteko y también parte de ella la más relevante en la fiscalía y también

de la comisión de seguimiento difícilmente podrá usted relatarme un proceso de esta comunidad o de cualquier otra que haya puesto más documentación

más transparente otra cosa es si hemos llegado donde usted quiere o no pero eso es

en relación a las tres cuestiones concretas a las que ha hecho referencia le diré

y son los mismos no son otros que esclarecer lo sucedido y tomar las medidas oportunas

para mejorar y solventar aquello que no ha funcionado bien y también para diseñar un nuevo modelo de ope más acorde

un modelo que contribuya a seleccionar los mejores profesionales garantizando los principios de igualdad de oportunidades y transparencia como usted ha mencionado el próximo lunes presentaremos en la comisión de salud una propuesta de modificaciones de los procesos de selección y de reordenación de la dirección

dando así cumplimiento por otro lado a un mandato de esta cámara a una moción que fue aprobada con el conjunto de los grupos

y creo que ha mencionado cuatro veces mire

a su lado y otra cosa es que se prueben usted ha tenido las actas los expedientes y toda la información

deme el nombre y apellidos de las personas que han filtrado los exámenes y qué parte de ellas porque yo tengo la misma documentación que usted y créame que el que irá a la fiscalía

mientras tanto seamos respetuosos con los profesionales

y no hagamos afirmaciones ligeras solamente por rédito político en relación a la dimisión del gerente de emergencias por quien también me ha preguntado mire

su cargo por voluntad propia y yo no puedo más que respetar su decisión y agradecerle la labor realizada al frente del servicio de emergencias durante estos últimos años

por otro lado a lo largo de todas las legislaturas entre los más

y el departamento de salud en todas las legislaturas hay dimisiones ceses y nombramientos no puede ser

no ha adoptado ninguna decisión con respecto a unificar o no lo centros de emergencias al día de hoy simplemente vamos a analizar

en el marco de que estamos convencidos de que lo que no hay que tocar es un modelo de atención integral donde trabaje el departamento de seguridad y el departamento de salud y no creo que a usted esto le coja por sorpresa porque me he tomado de analizar cómo son los centros coordinadores en aquellas comunidades

pues bueno galicia con una distribución territorial mucho más amplia que la de euskadi tiene un centro coordinador castilla y león con una distribución territorial y población mucho mayor que la nuestra tiene un centro coordinador murcia solo tiene

tiene un centro coordinador y otro de respaldo y le voy a decir más

para decidir si hay un centro coordinador y otro de respaldo o tres pero sí creo que es mi responsabilidad junto con el departamento de seguridad de analizar cuál es el modelo

para euskadi por lo tanto no creo que a usted le parezca mal si es que el señor gerente de emergencias ha dimitido porque haya un centro coordinador

qué le voy a hacer pues solo hay un centro coordinador por lo tanto entiendo que esta mención igual usted no la debería

por último ha sacado usted a colación el cese de la directora de salud

voy a reiterar y creo que tengo credibilidad y responsabilidad para afirmarlo el cese de la directora de salud pública ha sido a petición propia y por motivo de su jubilación

dilatada carrera profesional dedicada a la sanidad pública y específicamente al campo de la salud pública en gipuzkoa y en el departamento de salud la decisión de la directora de jubilarse al cumplir sesenta y cinco años era conocida desde hace meses

y trabajadores de su dirección y por el resto de directivos del departamento de salud habla usted de violencia psicosocial

sea prudente yo no le voy a decir más sea prudente y vuelvo a repetirle

ha realizado su trabajo y se ha jubilado en el momento en el que ha cumplido sesenta y cinco años

referiré primero y usted sabe lo sabe tan bien como yo

oferta pública de empleo y no se trata de llegar hasta donde quiera llegar el partido popular señor consejero se trata de llegar hasta donde quieren los ciudadanos y los ciudadanos quieren que se llegue hasta el final

en su gobierno porque quieren seguir valorando a un servicio como es el servicio público de salud como de los mejores del resto de españa

como los mejores o de los mejores de toda españa y si usted este asunto

no lo esclarece no llega hasta el final si no asume las responsabilidades que usted

pero que corresponden y que le corresponden a usted sabe que se le va a quedar la sombra de la sospecha para el resto de la legislatura por lo tanto el dar carpetazo a esta ope a las irregularidades y las filtraciones

que dilucidan y por eso a veces lo ha puesto como escusa y lo ha intentado poner como para dar carpetazo

se producen en otros ámbitos en otras instancias y resolverán lo que tengan que resolver pero usted tiene otro ámbito de actuación especifico y todavía

señor consejero y eso es lo que pedimos los ciudadanos y queremos los ciudadanos al margen de que yo aquí pueda trasladar unas opiniones concretas siendo una representante

elegida por los ciudadanos señor consejero es que últimamente en osakidetza y el departamento parece la casa de los líos

los ceses y eso pues no sé si podrá ser casualidad o no

es que se acumulan los ceses y dimisiones de personas de no cualquier persona sino de responsables que tienen responsabilidades altas en la dirección de determinados servicios en el departamento de salud y osakidetza estamos hablando del director de emergencias

director de emergencias y sus razones pero es que su dimisión se ha producido

del servicio de emergencias por lo tanto la vinculación es obvia si no hay vinculación que usted no la ha desmentido aquí usted no ha dicho que ha dimitido un señor que llevaba trabajando muchos años pues sería muy buen profesional

si tanto tiempo llevaba desde el señor urkullu algo habrá pasado

haya tomado la decisión de dimitir tras un anuncio concreto de la unificación de un servicio algo ha tenido que pasar ahí señor consejero independientemente

el proyecto de mejora del servicio de emergencias y ahí no voy a entrar porque no es el objeto de esta interpelación pero no me negará que es mucha sorpresa que cuando se hace un anuncio en relación

gestión en un servicio concreto aparezca la dimisión del responsable demasiada casualidad y hombre por otra parte en este caso sí que no es dimisión ha sido cese así ustedes lo han recogido

y adicciones por jubilación pero es cese no ha sido una dimisión ha sido un cese también

de haberse conocido unas denuncias por violencia psicosocial casualmente se conoce en una semana no sé si al primer consejo de gobierno

de la señora dorronsoro pues también demasiada casualidad y sí señor consejero usted sabe tan bien como yo

que estas situaciones eran conocidas desde hace tiempo y que la actual directora de osakidetza anterior responsable y que podía haber tomado

no se tomó en definitiva señor consejero la pelota está en su tejado usted sabrá lo que tiene que hacer usted

desde la responsabilidad que obtenla y yo me hago cargo de que

nadie sabe usted es el que sabe lo que tiene que hacer para que la sombra de duda que en este momento pende sobre osakidetza no se haga más grande usted tiene que tomar decisiones
en cuando a llegar al final y en cuanto situaciones concretas eskerrik asko garrido andrea

noski mire estoy convencido de que usted

conmigo muchas actuaciones con independencia de las diferencias políticas que nos separen sinceramente la dimisión o jubilación de una o varias personas en la organización personas que realizan su trabajo

en estas si quiere usted los datos se los doy pero publicamos cada plaza en el boletín oficial del país vasco y por lo tanto

pero lo cierto además es que forman parte de las circunstancias que debemos afrontar y superar para continuar garantizando una asistencia sanitaria pública universal y de calidad y que es lo que estamos

para mí es respetable que el gerente de emergencias presente la dimisión es muy respetable más respetable que que se quede si es que no está conforme

todos mis respetos sin embargo estoy segura de que usted y yo no compartimos que alguien deba de dimitir

un proyecto de estudio o de unificación del servicio de emergencias en un país

en que yo no voy a cuestionar cómo gestionan ustedes otras comunidades autónomas pero en esto son un ejemplo de centro coordinador único por lo tanto

pues entiendo que si presenta la dimisión porque tienen un centro pues le dirán ustedes qué le vamos a hacer

cesó por jubilación y en el papel que ha leído usted le ha faltado leer cese a petición

cese a petición propia porque eso es lo que aprobó el gobierno créame mire en el ámbito de la ope puedo estar de acuerdo con usted

pero también respéteme que desde el mes de junio estamos trabajando día a día con celeridad y diligencia para investigar lo sucedido

sean realmente a las que les corresponden porque yo también he visto en este parlamento pedirme que anule todas que anule diez que anule solo las de médicos que repita todo que no repita nada

me encuentro ante una situación francamente complicada donde

el que lo gestiona tiene que respetar la legalidad y el procedimiento administrativo porque

es relativamente sencillo como conoce y he dicho anteriormente el próximo lunes

el mandato del pasado veintiuno de julio en esa misma comparecencia presentaremos además el informe realizado por un experto que recoge las propuestas y recomendaciones

una propuesta abierta al debate de los grupos parlamentarios con quien esperamos poder mantener un debate constructivo con el objetivo de definir de manera consensuada los criterios y características del nuevo modelo de ope y luego mis propósitos están claros están claros

terminar mi trabajo con respecto a esclarecer definitivamente lo ocurrido en la ope repetir aquellas pruebas que los propios tribunales han determinado que se repitan ser transparentes con ustedes como creo que estamos siendo poner también toda la información al ararteko que tiene otro ámbito de responsabilidad y a la fiscalía como hemos hecho y cuando acabemos
si hay que tomar alguna responsabilidad la tomaremos eskerrik asko darpón jauna

sailburuak compañeros y compañeras parlamentarias yo solo cuatro minutos señor consejero no se preocupe

en una reunión en emergencias de gipuzkoa

para comunicarle que aceptaba su cese la pregunta es sencilla

ese cese tiene relación con un proyecto de unificación

y tampoco tengo ni idea de quién le pudo llamar seguramente muchas personas

ese aspecto y no soy capaz de respondérselo en cualquier caso por qué ha dimitido el señor unanue

señor consejero a mí solo me tiene que escuchar cuatro minutos

a mí trátame por favor con mucho respeto y con mucha tranquilidad mire dice san ignacio de loyola en la quinta regla

en tiempos de cambios no es conveniente hacer mudanzas

en tiempo de tribulaciones en tiempo de desolación

aún está sin cerrar los problemas de las ope fraudulentas el convenio de vinculación del onkologiko de donosti los planes de potenciación de la atención primaria y se mete usted en un proceso

porque la verdad es que agradezco infinitamente sus palabras como agradezco a la parlamentaria blanco pues

no me voy a repetir voy a plantear unas pinceladas y voy a enfocar el tema de otra manera en este

tiempo que tengo en la opinión de nuestro grupo es un desacierto el tema de la unificación y si usted tiene evidencia científica de que hay modelos de centralizar la coordinación de emergencias a nivel internacional

están planteando sistemas de descentralización pero bueno es posible que el estudio que usted está haciendo demuestre lo contrario porque el asunto como yo quiero enfocar esta pregunta es que hay un problema de información

haya un problema de transparencia y esto crea conflictos innecesarios en organización

en los centros de emergencias lo ha explicado eva blanco perfectamente en qué consiste su actividad son asuntos de decisiones críticas

para abordar procesos de atención urgente en cada territorio aun no se conoce

ni el plan de unificación supuesto y todos los sindicatos están en contra algo no va bien

a qué viene que todos los sindicatos estén en contra cuando todavía no sabemos si es un estudio

más de cincuenta profesionales deberían desplazarse a bilbao sin duda ha condicionado las reflexiones que está haciendo osakidetza como usted bien sabe sos deiak ya decidió hace un año trasladar

de accidentes en mi opinión es un problema de no solamente negociación laboral

implicados en el tema qué es lo que quieren hacer y hágalo en los momentos adecuados porque yo

escuchar a la gente escuchar a los agentes sociales escuchar a las plantillas

uria jauna tiene usted todo mi respeto y mi amistad y lo sabe además

mucho más contento porque realmente no hubiera sospechado yo que soy

lo cual lo celebro me parece una lectura francamente recomendable incluso desde sus posiciones mire

un país con dos millónes

kilómetros cuadrados cuántos centros de coordinación de emergencias necesita en el siglo veintiuno con la tecnología disponible

si es tres si es dos si es uno y evidentemente que condiciona la posición del departamento de seguridad

voy a defender mientras sea consejero un centro o varios centros de coordinación pero siempre integrados no separados cosa

y las culturas de la ertzaintza y las de osakidetza se parecen poco

es compleja si es por los trabajadores estarían separados desde hace treinta y cinco años

sí no tengo yo ninguna duda mire yo respeto la democracia

en base a la participación global de todos ellos me han puesto

un centro de referencia funcione en el día a día y se adapte a las necesidades futuras que tienes que hacer hoy para que mañana esté bien y luego que el modelo de centro coordinador que tenemos y creo que funciona bien tiene treinta y cinco años la misma edad que osakidetza que es de mil novecientos noventa y tres y luego yo también le agradezco a la señora blanco que no está en este momento que se ha tomado la molestia

el trabajo que ha hecho pero realmente y lo digo con sinceridad creo que el debate sale hoy en el diario vasco

está más en las condiciones laborales que me parecen respetables

de los modelos de coordinación mire ustedes solo participan en el gobierno de momento de una comunidad castilla la mancha supongo que llamará usted esta tarde al consejero de salud y al consejero

que está completamente equivocado porque es que tiene un centro coordinación

por lo tanto si desde elkarrekin podemos entienden que con un país de nuestras características necesitamos más de un centro coordinador que le repito yo lo voy a estudiar porque no lo sé no hay ninguna decisión tomada

pues entonces aplique aplique pero no me venda a mí consejos

venga a defender a los trabajadores y la respeto pero eso es lo que ha hecho eskerrik asko

señor retortillo buenos días como usted sabrá hace más de un año hace poco más de un año

y se publicó por el gobierno de españa un real decreto apoyado por el partido socialista por ciudadanos y por el partido popular que regulaba el bono social eléctrico esta regulación este real decreto el ochocientos noventa y siete barra dos mil siete tiene una disposición transitoria primera que es toda una trampa todo un fraude para miles de personas beneficiarias del bono social

seis meses no renuevan su solicitud se quedan sin ese bono social eso supone que después de varias prórrogas

miles de personas en todo el estado y también en euskadi se van a quedar sin el bono social sin saber ni siquiera que tienen que renovarlo

no está al día del boletín oficial del estado entonces yo no le voy a interpelar como miembro del partido socialista responsable

es una entidad que tiene que defender

procurar informar a las personas consumidoras de todo lo que sucede

a estas personas beneficiarias de en qué circunstancias se encuentran y se van a encontrar el uno de enero eskerrik asko becerra jauna erantzuteko retortillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea señorías señor becerra en realidad el plazo de seis meses a partir del cual había que renovar por petición expresa

ese plazo de seis meses se iniciaba con la publicación de la orden que extendía el decreto de octubre del

en el que se especificaba el formulario de solicitud ese plazo como sabe comenzaba

de este año que fue cuando se publicó esa orden y finalizaba el ocho de octubre

la prórroga que ha extendido hasta el treinta y uno de diciembre el plazo además de incluir otras garantías para colectivos vulnerables se debe al decreto que en octubre de este año el gobierno socialista ha publicado como seguro conoce por lo tanto el plazo acababa el ocho de octubre en relación

en kontsumobide el presupuesto que tiene para realizar campañas de comunicación y sensibilización por cierto ayer salió la cuestión en la comisión de presupuestos es un presupuesto es público

ayer propuse proponía en mi proyecto un aumento

euros y precisamente fue la compañera de su grupo a la que llamó la atención ese ascenso y le dije efectivamente un argumento que usted ha utilizado no todo el mundo accede a la información y a la labor que proyecta en la defensa de los derechos de los consumidores

a través de su página web o de acudir personalmente de manera proactiva a las oficinas

es importante hacer ese tipo de campañas bien con ese presupuesto con ese corto presupuesto la campaña de comunicación que se permite el instituto vasco de consumo es una campaña anual la campaña de publicación en medios

y que básicamente consiste en cuñas de radio porque obviamente con ese presupuesto no llegamos a anuncios de televisión

la planificación de medios se licitó el ocho de agosto los contenidos fueron definidos y desarrollados por el propio equipo de comunicación del departamento además de la dirección de kontsumobide y en este caso una campaña que se iniciaba el tres de septiembre

que abría la orden de extensión del decreto el tres de septiembre esa campaña incluía varios contenidos en forma de cuñas

sistema arbitral de consumo y bono social eléctrico y la campaña hablaba específicamente en esa cuña desde el tres de octubre en relación a eso bien qué hemos hecho o qué proponemos de modificación aumentar a partir del quince de noviembre la frecuencia de esa cuña además de

pero la campaña ya se venía haciendo en esa campaña genérica de comunicación a los consumidores nada más muchas gracias eskerrik asko

pero no es tanto la cuestión del dinero sino la de la voluntad y yo me alegro de que usted haya reconocido aquí que

y que a lo mejor me ha parecido entenderle se incrementará la frecuencia de la cuña del bono social

cientos o miles de personas que van a ver desde el treinta y uno de diciembre cómo su factura se ve incrementada justo se ve incrementada en la época en la que más

ni siquiera se van a dar cuenta de por qué les sube la factura van a pensar que es por razón del invierno y para cuando se quieran dar cuenta les han pasado dos tres o cuatro meses

que no pueden pagar y luego van a venir los cortes eléctricos porque usted sabe que quien no es beneficiario del bono social

lo suficiente como para que le pongamos manos a la obra me gustaría que efectivamente las cuñas de radio intensificaran en el sentido de avisar

su página web advierte de cómo se puede pedir el bono social pero en su página web no se dice nada del treinta y uno de diciembre no se dice nada

pero también tenemos los ayuntamientos qué están haciendo los ayuntamientos que gestionan las ayudas de emergencia por ejemplo para dar esa información

se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer muchas cosas lo único que no nos podemos hacer es

que va a sufrir las consecuencias y yo sé que el gobierno socialista a través del decreto a que se ha referido usted de octubre ha intentado paliar

tratando de a través de una orden que regulaba los formularios dejar indefensas a cientos o miles de personas como a día de hoy
va a suceder nada más muchas gracias eskerrik asko becerra jauna retortillo jauna

eskerrik asko presidente andrea señor becerra sin alharacas sin excesos el tres de septiembre empezó la campaña con la cuña del bono social el plazo acababa de octubre dónde estaba su pregunta entonces el tres de septiembre empezamos nosotros a hablar de esta cuestión a publicitarla en medios en esta cuestión y además hemos tenido talleres formativos hasta dieciséis sobre pobreza energética
hemos comunicado a través de la web hemos hecho blog y hemos hecho dos cosas y claro que hemos informado de los cambios eskerrik asko

buenos días muchas gracias presidenta consejera consejeros

hace unos días tuvimos la oportunidad yo creo que todos los grupos parlamentarios de tener

la cuestión del remonte de su organización del juego de las competiciones y nos expusieron una serie de dificultades

modalidad única respecto a otros deportes relacionados con la cesta

remonte tiene más de ciento diez años de práctica en frontones

de otras provincias españolas y se practica con la cesta que le da nombre a la competición o juego en la actualidad pues fundamentalmente en gipuzkoa en el galarreta de hernani en navarra en el euskal jai berri de

se practica esta competición fundamentalmente y vuelvo a decir que hace pocos días en el parlamento vasco hemos podido recibir a representantes de la empresa que en euskadi mantiene viva la llama de esta práctica deportiva y de la organización de la competición y nos han trasladado

para mantener la práctica de la modalidad debido a diferentes razones

bien conocido o ligados al deporte de la pelota vasca y en ese sentido pues le preguntamos a usted si tiene intención de abordar actuaciones y apoyos de cara

algún tipo de apoyo o de medida o de plan de viabilidad

presidente andrea legebiltzarkideok barrio jauna pues sí teníamos conocimiento de que los representantes de la empresa

han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios de esta cámara y esperaba esta pregunta las últimas reuniones que mantuvimos con ellos

nos hacían pensar que recurrirían a ustedes para persuadir al gobierno y así ha sido

conscientes de las dificultades que atravesaba la empresa oriamendi dos mil diez para mantener un cuadro de remontistas estable y con el objetivo de ayudar a mantener vivo esta modalidad que lleva ya décadas

tras una serie de reuniones mantenidas con la empresa acordamos conceder a la misma

para cada una de las anualidades de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete finalizado el plazo acordado nos encontramos con que la situación no había mejorado en anda y antes las dificultades con que se encuentra

que mantuviéramos la subvención y créame lo más fácil para nuestro departamento habría sido no darles una negativa y perpetuar en el presupuesto de deportes una ayuda nominal pero estamos convencidos de que con esta decisión no habríamos contribuido en nada a resolver

por cierto un estado parecido al de otras modalidades de la pelota vasca la web de la federación vasca documenta cinco modalidades de juego de pelota

y dentro de cada una de ellas un número elevado de especialidades que se pueden jugar

trinquete o plaza libre mano cuatro y medio mano a mano parejas pala

mano a mano en parejas joko garbi cesta

remonte individual o en parejas pasaka xare

muchas de estas modalidades tienen una actividad muy limitada y esta se concentra

enclaves geográficos su supervivencia a nivel competitivo es muy complicada en un entorno

su mantenimiento en términos de competición está necesariamente ligada a la existencia de empresas cuadros profesionales y un sistema de juego y apuesta en el frontón que lo haga viable y su aprendizaje y continuidad dependerá en gran medida de lo que las escuelas de pelota

o consideren factible y del interés que estas especialidades minoritarias puedan suscitar en los seguidores más jóvenes

el único municipio de la comunidad autónoma vasca en el que existe un frontón de remonte el otro está como ha dicho usted en navarra uharte

de galarreta y de cómo se vaciaban los autobuses interurbanos que transportaban a las personas y también

de corredores no es un tema fácil probablemente

cuáles son las modalidades que se pueden mantener en una categoría profesional y seguramente el futuro de muchas otras deberá realizarse en un entorno amateur

una decisión social eskerrik asko eskerrik asko

bien está claro bueno gracias por su respuesta está claro que

son varias efectivamente ha llegado la cuestión a donde la tenemos ahora ellos también nos comentaban que sí que es cierto que hubo contactos con el gobierno vasco y que se aprobó alguna parte alguna subvención pero que por ejemplo la del dos mil diecisiete pues no se materializó no se tramitó y bueno

hay que ver un poco las características especiales del deporte son unas características especiales que bien hay otras características comunes con otros de los deportes de la pelota vasca pero tiene unas características especiales en relación con las necesidades del frontón

determinadas cuestiones que tienen que ver con la técnica con el instrumento utilizado bueno o sea que

paralizado el otro día vimos en la prensa en el diario vasco cómo hay remonte después de ezkurra el gran pelotari y

se presentaba el campeonato dos mil dieciocho y entre ellos algunas de las fundaciones que también apoyan al deporte que es la fundación usted siendo de hernani orona fundazioa

apoyaba decía que prestamos nuestro apoyo al remonte porque es un patrimonio inmaterial ahora que estamos hablando de la ley del proyecto de patrimonio pues bueno hay esa consideración yo creo que alguna habrá que buscar está bien claro que usted se ha referido a otras modalidades deportivas y otras modalidades deportivas están bien apoyadas por su gobierno por la euskal telebista

pues está bien claro que está apoyado por las retrasmisiones de etb y a parte por la asistencia por las apuestas efectivamente

de bizkaia tiene un apoyo a esta modalidad

el gobierno vasco precisamente lo apoya la

entendemos que tiene que haber una reflexión y que lo que ellos piden como apoyo no es mucho haga una reflexión por favor eskerrik asko barrio jauna

cómo en los últimos años está aumentando notablemente el número de salones de apuestas y con ello el número de personas con problemas con la ludopatía en euskadi

y que aumenta especialmente entre los jóvenes de dieciocho a veinticinco años los datos del ministerio de sanidad apuntan a que las apuestas son el segundo caso de ludopatía por detrás de las máquinas tragaperras ya que los índices de esta adicción en los menores de veinticinco años

de un seis por ciento a un veinticinco por ciento gure taldea oso kezkatuta dago azken aldian euskadin ematen ari den kirol apustuen

hace diez años nadie sabía de ellas no existían pero en este tiempo se han expandido con apariencia inocua por todo euskadi las calles y los barrios de nuestros municipios se han llenado de casas de apuestas y de salones de juego por todos los lados la proliferación

también a nuestros municipios situándose salones de juego en lugares de especial sensibilidad en las cercanías incluso

con la consiguiente exposición de las alumnas y alumnos al juego

que puede desembocar en problemas de adicción el casino

contra las apuestas deportivas que les han comido el terreno en poco tiempo a esto juegos las asociaciones que luchan contra la ludopatía

y advierten del peligro de una situación que se agrava día a día al tiempo que se extiende esta forma de ocio entre la ciudadanía vasca

que se practica de forma frecuente en eventos deportivos como las regatas

se alzan las voces de colectivos y expertos que advierten del peligro que puede suponer esto para los jóvenes en cuatro años ha habido un crecimiento de un trescientos trece por ciento en las apuestas deportivas a nivel estatal y se prevé que en dos mil dieciocho

actualmente el perfil de personas que acuden a asociaciones a solicitar ayuda por problemas con el juego

pero son los chavales de once doce trece y catorce años

los que tienen un gran riesgo según apuntan desde los colectivos que luchan

del juego es una evidencia el crecimiento desproporcionado en los últimos tiempos de espacios físicos

tanto de apuestas deportivas como las de juegos como el póker o el bingo por nombrar algunos que hasta ahora requerían desplazarse hasta alguna sala o casino

en plataformas digitales y medios de comunicación nos bombardean constantemente

copan espacios publicitarios con las caras más populares del momento y utilizan a los ídolos deportivos para despertar en personas cada vez más jóvenes que tienen a un golpe de clic en el móvil en la tablet o en el ordenador la posibilidad suerte además estas empresas son las patrocinadores principales de muchos equipos deportivos diecinueve diecinueve de los veinte equipos de la liga de futbol de primera división tiene algún acuerdo con empresas de apuestas para su patrocinio al igual que pasa

y en otras disciplinas el tópico dice que las vascas hemos sido tradicionalmente dadas a todo tipo de apuestas y los datos confirman el tópico las cifras son inabarcables

según la dirección del juego del gobierno vasco que como bien sabe la consejera de seguridad depende directamente de su departamento

casi trescientos cuarenta millónes de euros en apuestas deportivas con una apuesta media de nueve euros

cada segundo y estamos hablando de los datos de las tres empresas que se dedican a las apuestas deportivas en euskadi fuera de estos datos quedan todas las empresas

es bastante superior y se trata por supuesto de un negocio lucrativo en el juego ya se sabe como en el tribunal supremo la banca siempre gana

y los premios que se conceden un negocio que además crece

netos de las empresas un trece por ciento y un ochenta por ciento si lo comparamos con el año dos mil doce el negocio está servido y desde los colectivos y asociaciones como ekintzabide denuncian

con problemas serios de adicciones en las apuestas deportivas así como muchos padres de menores para solicitar ayuda al encontrarse boletos en los bolsillos de sus pantalones para elkarrekin podemos la situación es grave y en necesario tomar medidas y abordar desde las instituciones planes y campañas que palien el impacto negativo del juego las apuestas y sus consecuencias negativas

en lo que se refiere a la protección de los colectivos más vulnerables como son los niños las niñas y los jóvenes en el caso de euskadi se elabora una encuesta periódica para conocer el estado de la situación sobre el consumo de drogas y otras adicciones y sustancias denominada euskadi y drogas

tal y como reclaman expertos en adicciones y asociaciones resulta imprescindible

ya que la ausencia de información imposibilita cuantificar la realidad de la ludopatía en euskadi expertos en adicciones y asociaciones así como el análisis que hace

como adicción comportamental sobre todo entre los jóvenes que acceden a las apuestas a través

que generan conductas compulsivas y dependencia y que la emergencia de los nuevos canales que facilitan el acceso al juego son un riesgo sin embargo las acciones planteadas al respecto son escasas

que nos ofrezcan una fotografía detallada y exhaustiva de la situación actual del juego y las apuestas deportivas y del número de personas afectadas

los partidos de la oposición entre ellos elkarrekin podemos solicitamos la creación de un observatorio de juego como uno de los primeros pasos a dar para realizar de una forma periódica encuestas y estudios

sobre el que trabajar para abordar esta problemática una vez más el gobierno vasco al que usted pertenece

y antes de que la iniciativa se debatiera en esta cámara que si no me equivoco será tratada en el próximo pleno

aprobaron ustedes deprisa y corriendo un decreto para la creación del observatorio del juego para colgarse una medalla más que tanto les gusta a ustedes lo que no entiendo es por qué si ustedes eran conocedoras de la necesidad de habilitar y crear este nuevo órgano no han sido capaces de hacerlo hasta ahora y han esperado a que los demás lo pongamos encima de la mesa

que tanto les importa en todo caso para elkarrekin podemos el observatorio del juego es la primera de las medidas que han de ponerse en marcha para abordar la situación del juego en euskadi hay mucho trabajo que realizar partiendo de una coordinación

y en todos los niveles administrativos en colaboración con las asociaciones y colectivos que luchan contra la ludopatía y otras adicciones derivadas

las administraciones públicas deben asumir esta situación por lo tanto se requiere que el gobierno vasco asuma un papel protagonista en la materia del mismo modo que los ayuntamientos tienen una gran responsabilidad a la hora de crear instrumentos para proteger a la población más vulnerable y garantizar el bienestar del conjunto de las vecinas y vecinos de los municipios de euskadi

la siguiente pregunta qué otras medidas de prevención y limitación de las consecuencias negativas del juego va a adoptar el departamento de juegos y espectáculos para proteger a la población más vulnerable

y apuestas deportivas en euskadi eskerrik asko

señora garcía para este gobierno es importante conocer en profundidad y disponer de medidas reguladoras y preventivas para evitar que personas familias y colectivos sufran estos problemas de adicción que usted ha enumerado de adicción al juego

regulación del juego presencial en casinos en salones de apuestas en bingos y también en otras modalidades de juego presencial somos también competentes en

actividades de ámbito dentro de nuestra propia comunidad desde nuestro ámbito competencial le puedo decir que hemos sido pioneros en la regulación del juego y también en la adopción de medidas de prevención y de control mire desde la

hasta hoy mismo siempre nos hemos destacado por regular y controlar las actividades lucrativas de juego

caigan en este tipo de adicciones ahora desde la aprobación del reglamento general de juego creo que incluso puedo decirle que tenemos mejores herramientas para

por ejemplo herramientas como ha comentado usted la aprobación del observatorio

recientemente aprobado pero no porque fuera una iniciativa suya del partido del grupo podemos sino porque es una preocupación y era una iniciativa del propio departamento porque usted sabrá perfectamente que

por tanto no se trata además de colgarse medallas

medidas que vayan paliando precisamente este tipo de situaciones pero tampoco le voy a ocultar que en este contexto de la globalización donde muchas de las actividades

cada vez está más asociadas al uso de internet hay plataformas medios que

espacios con facilidad y al mismo tiempo que sobrepasan nuestro ámbito competencial somos conscientes de que la publicidad con relación a la promoción del juego y el acceso a productos de juego publicitarios va

y cada vez van a más la práctica totalidad del juego online reside se desarrolla y explota comercialmente desde

exteriores desde dominios web fuera de nuestro

entran en conflicto que es la publicidad y el juego online pero que además esos elementos necesitan de otros sistemas de control pero dicho esto también hay que destacar lo que ya también se nos reconoce tanto desde el mundo de la

del juego como también por parte de las asociaciones que atienden a las personas que sufren adicciones comportamentales como son las ludopatías

actividad del juego se desarrolle dentro de unos cauces de regulación y control actualizados importantes y también eficaces disponemos de una reglamentación integral avanzada pionera en nuestro entorno insisto pionera en nuestro entorno que fija pautas de actuación y normas

a las personas jugadoras como eje central de toda la normativa el reglamento nos permite gestionar un registro central de juego para su conocimiento y también nos permite la organización a través del consejo vasco del juego establecer esos estudios coordinación y consulta con todo lo que está relacionado con el sector del juego asimismo hay una comisión técnica que examina canaliza las sugerencias y propuestas que pueda haber en torno al tema los cambios normativos cómo afectan al sector y también la promoción de iniciativas destinadas al juego responsable

este aspecto el del juego responsable en el que tanto incide el reglamento nos parece de vital importancia porque nos conduce sobre todo a incidir en los riesgos que conlleva la afición al juego siempre que perdamos el control sobre él

desde dinámicas de concienciación permite combatir de una forma preventiva estas posibles adictivas algo que adquiere especial relevancia con el estatuto de la persona jugadora que se recoge también esta figura

reglamento hablamos del derecho que tiene cualquier persona a identificarse de modo seguro del derecho a ser informado o informada en los establecimientos de las buenas prácticas de juego responsable

lo que supone que puede uno o una autoprohibirse el acceso a determinados locales de juego desde esa misma filosofía regulatoria el decreto también establece la responsabilidad social de las

responsabilidad que está basada como en todos los casos en valores éticos y de transparencia responsabilidad que incluye principios que tiene que regir siempre la actuación de las empresas del sector por ejemplo la obligación que tienen las empresas los titulares de los locales de juego

web de ofrecer a las personas usuarias información sobre la naturaleza de los juegos que se ofrecen también riesgos que el exceso de la actividad conlleva información sobre los posibles efectos que una práctica no adecuada de juego puede tener fomentando de esta manera obligaciones también las advertencias sobre qué ocurre cuando no hay

juego responsable cuando no hay o se va al juego de una manera compulsiva de una manera no consciente es decir que este estatuto recoge esas obligaciones recoge también la obligación

su personal cursos de formación orientados al juego responsable y la obligación de exhibir de forma visible ante el público

sobre las reglas del juego responsable conforme al texto y al formato que están facilitados por la autoridad reguladora del juego

de establecer campañas de formación campañas de sensibilización campañas preventivas campañas educativas incluso

de salud con el departamento de educación o con el departamento de políticas sociales

otra institución que trabaje para combatir cualquier tipo de riesgo de conducta

tenemos por tanto la obligación de que la actividad económica que va asociada al juego y justamente la pregunta anterior tenía que ver con el juego

convivan en un equilibrio dinámico constante entre los derechos y los deberes de las dos partes implicadas quien ofrece el juego y quien juega

en el que el norte de nuestras preocupaciones y obligaciones esté siempre orientado a la prevención y a la asunción del juego desde actitudes responsables tal y como queda recogido efectivamente y como se establece en el observatorio vasco del juego un observatorio que va a ser una

esos objetivos que perseguimos una herramienta importante que nos va a permitir seguir trabajando y seguir profundizando en la adopción de medidas de prevención y de control del juego responsable son tres líneas de trabajo fundamentales en las que se orienta el observatorio por una parte recogida de información el análisis y estudio y también la divulgación precisamente de medidas que eviten la al juego es decir la difusión y la concienciación sobre la necesidad de un juego responsable en el gobierno somos muy conscientes de los riesgos que tiene el juego y por eso vamos adoptando medidas

efectivamente y usted lo ha dicho aquí cuando se pierde el control sobre él puede llevar a

y a veces trágicos pero también las personas tienen derecho a jugar por tanto tenemos que buscar el equilibrio entre ambas cuestiones establecer las medidas necesarias suficientes que garanticen y que eviten o que minimicen esos riesgos y también garantizar que la actividad económica se desarrolla de una forma responsable y de una forma segura eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señora beltrán de heredia es verdad

la regulación y en la delimitación de los salones y los espacios también fuimos pioneros porque fue en bilbao donde se abrió el primer establecimiento

una máquina de apuestas y sin embargo no es suficiente y es necesario avanzar e ir más allá de las normativas actuales por muy

el gobierno vasco active medidas y ponga en marcha acciones que limiten la proliferación de estos espacios y regulen por ejemplo la distancia entre los mismos con respecto a los centros educativos

de la comunidad autónoma de euskadi una limitación de apertura de nuevos locales

y concentración de estos espacios en las mismas zonas para nosotras es importante que se establezcan condiciones preventivas a las características de los salones de juego

visibilidad y accesibilidad a la información preventiva que sea obligatorio el uso de cartelería dentro de estos espacios que especifique de forma clara las consecuencias negativas que puede producir la adicción al juego y a las apuestas deportivas otra de las peticiones de las asociaciones y colectivos que luchan contra la ludopatía

la de que se pongan en marcha más campañas de sensibilización y se incluya la información sobre las consecuencias negativas del juego en campañas escolares

además hay que aumentar el apoyo de las administraciones públicas a estas asociaciones que reciben a personas con trastornos derivados del juego y que evidentemente

el número de usuarios que acuden a ellas por eso también de alguna manera habría que garantizar servicios públicos de atención integral de las ludopatías

el último estudio que se realizó y en eso coincidimos en la necesidad de la creación de un observatorio de juego

y la campaña que nosotras encontramos en la página web realizada por la dirección de juegos y espectáculos data del dos mil diez es evidente que es necesario avanzar más en esta materia tanto en la recopilación de datos y monitorización de la evolución del juego

está bien lo que hemos hecho pero es evidente que hay que avanzar más ante la coyuntura actual

por otro lado el gobierno vasco cuenta con el registro de interdicciones de euskadi que recoge las personas que se han auto prohibido jugar o las que se les ha prohibido jugar por algún altercado en alguna sala

de auto prohibidos con la unificación imprescindible de todos los registros autonómicos en un registro central

además hay que abordar la cuestión de que usted hablaba

plantear el reforzamiento dentro de los propios agentes de seguridad de la formación

relacionadas con las apuestas y el juego particularmente en el acceso de menores de edad personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego legalmente restringido y por último en lo que respecta a la publicidad y promoción de los portales

hay que limitar su presencia en los medios públicos vascos asimismo el gobierno vasco debería comprometerse

no consten como patrocinadores estas empresas no creo que sea un compromiso tan complicado y sí que creo que están en nuestras y en sus manos

a caer en las consecuencias negativas del juego a través de la prevención y la aplicación de medidas de control y sensibilidad de la sociedad más medidas de control

de algunas empresas del sector por lucrarse y obtener beneficios sin importar las nefastas consecuencias de un uso irresponsable y en ese camino nos encontraremos mila esker

eskerrik asko mahaiburu andrea me deja usted sorprendida primero porque me ha hablado de que sería bueno que el registro

estuviera intercomunicado y estuviera a nivel de todas las comunidades existe un registro nacional de auto prohibidos donde

lugar del estado por tanto eso está me ha hablado de que sería bueno que en los salones de juegos en determinados locales hubiera

consecuencias nefastas del juego le he comentado que existe esa obligación de realizarse

juego ilegal promover el juego responsable y tratar de minimizar ese

realizando de forma sistemática actividades de control y de sensibilización y con este fin se han elaborado

manuales específicos de buenas prácticas de juego responsable para distintos locales y operadores en colaboración con la asociación alavesa de jugadores en rehabilitación con la fundación etorkintza que trabaja con personas con problemas de se ha creado y difundido un videojuego interactivo educativo orientado y destinado a menores un videojuego que está accesible en la página web de la

pero además de regular y sensibilizar como departamento también somos responsables de los mecanismos de control y de vigilancia

esta unidad es la encargada de ejecutar en la práctica el plan de inspección que anualmente se elabora desde el departamento y que se

hay datos que dan buena cuenta precisamente de la labor que realiza esta y que persigue cualquier tipo de infracción en el sector del juego la unidad inspecciona anualmente al menos al veinticinco por ciento de las maquinas existentes en establecimientos

inspecciona la totalidad de los locales de apuestas salones de juego bingos casinos sus elementos de juego y los motivos de apuesta la ertzaintza en dos mil diecisiete efectuó más de tres mil inspecciones

de toda esa labor inspectora se desprendieron en total cincuenta y siete expedientes sancionadores veintitres por incumplimiento en horario de cierre

con relación al control y vigilancia del juego de menores el departamento

en dos mil diecisiete una instrucción específica una instrucción del viceconsejero de seguridad con la cual se incrementaba la vigilancia con la implicación de otros cuerpos policiales y sobre todo con el control para evitar que menores accedan a locales

se elaboró el segundo libro blanco de juego también está publicado también hemos sido pioneros en regulación y planificación integral que limita el número máximo de locales de juego del territorio que marca las distancias mínimas exigidas

está publicado toda esta regulación y su aplicación permite asegurar que en euskadi no podrán darse las situaciones las problemáticas que se están dando en otros puntos del estado

o gran número de locales de juego en áreas muy concretas y muy próximos entre ellos

como le digo por las distancias que están establecidas entre locales de juego

también la publicidad de actividades de juego en nuestro ámbito se encuentra bajo control y competencia del gobierno vasco con la aplicación de la normativa expresa incluida en la reglamentación de juego

la problemática que conlleva el que la ciudadanía vasca reciba la publicidad de juego que sobrepasa nuestro ámbito de competencia normativa avanzada medidas sistemas medios de control y gestión corresponsabilidad del sector

prevención para un juego responsable y medidas estrictas para que los menores puedan acceder al juego vamos a seguir trabajando para tratar de reducir para que la lacra de las adicciones

lo haremos también como lo estamos haciendo hasta ahora en coordinación con el departamento de salud con el departamento de educación y con

que adoptemos tenemos que integrarlas en todos los sectores tenemos que trabajar conjuntamente y sobre todo tenemos que minimizar como le digo al mínimo el riesgo de conductas adictivas y en ello estamos trabajando y creo que queda buena muestra del trabajo realizado eskerrik asko

gai zerrendako hogeigarren puntua galdera javier ruiz de arbulo

gracias señora presidenta señoras consejeras señorías buenos días de nuevo señora beltrán de heredia

es la sustitución de todos los vehículos patrulla porque los que

y para ello tras un largo y tedioso proceso de licitación se han adquirido mediante un arrendamiento financiero más de trescientos vehículos la mitad de ellos con mampara de separación para el transporte de detenidos y otros

cuando llegan los primeros vehículos a las comisarías empiezan a llegar las quejas de los agentes yo sé que llegan las quejas de los agentes a sus propios mandos porque a nosotros nos llaman agentes a título particular y nos cuentan que tiene problemas en este caso señora consejera el tamaño sí es importante

tienen problemas para entrar y salir del vehículo y para ocupar la posición de conducción normal del vehículo ciento setenta y cinco cm de altura pero es que los asientos envolventes que vienen de serie en este vehículo

correaje y además el soporte de seguridad del arma reglamentaria con lo cual la mayoría de los agentes tienen problemas para el uso de estos vehículos se quejan

bueno ante esta situación y como estoy seguro de que a usted

ya de manera formal lo que quiero saber señoría estos vehículos cumplen los requisitos de las bases de licitación es decir

están dentro de lo que se sacó a concurso y existen

me da lo mismo del servicio de prevención de riesgos laborales del departamento

de la academia de policía y emergencias que avalen la idoneidad ergonómica de estos vehículos para los agentes muchas gracias eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea señor ruiz de arbulo

estamos a punto de concluir ya la renovación del parque

y como usted sabe también de miñones se han adquirido en renting ciento cuatro coches todoterrenos modelo toyota land

furgonetas mercedes vito para tráfico trescientos coches patrullas seat león

ciento cincuenta caballos de potencia son vehículos

manejabilidad potencia estabilidad y otra serie de prestaciones mecánicas responden adecuadamente a la actividad policial para la que están destinados

a determinados usos que son exclusivos de la actividad policial tanto los requerimientos técnicos como las necesidades de transformación están fijados y detallados en las bases de contratación como no podía ser de otra manera

todos y cada uno de ellos y sin excepción han superado

proceso de validación en el momento de su recepción en el departamento porque cuando no han cumplido por alguna de las causas los requisitos establecidos por menor que este fuera pero por mínimo se han revisado y se ha exigido al arrendador su corrección

aplicado todos ellos han pasado la inspección técnica de vehículos la itv obligatoria y evidentemente cuentan con la homologación preceptiva del ministerio de industria

evidentemente la constatación de que por fin hemos podido renovar la flota
de coches de la ertzaintza de una forma satisfactoria eskerrik asko

señora heredia debe ser satisfactoria para usted

por no entrar a que los armeros según ellos los ha debido diseñar el diablo porque debe ser complicadísimo introducir y sacar las armas de los mismos porque no tienen gps que ha sido anulado aunque venga de serie y no lo pueden utilizar para buscar una dirección donde tienen que dirigirse ojo

no tienen retrovisores interiores señora consejera a usted le parece satisfactorio todo eso va a hacer algo respecto de las quejas de los agentes o es simplemente que los malos siempre se están quejando contra la dirección de su departamento porque igual quien le traslada a usted la satisfacción de la renovación de la flota son precisamente los que se han encargado

toda la tramitación del expediente de compra pero habría que pensar en los miles de agentes que pasan cientos de horas al mes montados en

su puesto de trabajo y que no entran señora consejera que no entran de ancho

el soporte de la pistola no entran de alto aquellos que miden más de la altura a la que le he referido me parece que satisfechos aparte de usted y su equipo deben estar las marcas que han comprado esos vehículos perdón que les han vendido esos vehículos por los minutos de publicidad que les ha regalado hoy desde la tribuna pero los agentes no lo están

y utilicen los vehículos viejos gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

señor ruiz de arbulo beltrán de heredia por favor beltrán de heredia como buenos alaveses por lo menos

mire efectivamente usted ha recogido alguna quejas

como también me han llegado a mí comentarios quejas pero no tiene por qué coincidir necesariamente con la acogida que la mayoría de los y las usuarias de estos vehículos han dado a los mismos hemos recibido efectivamente una veintena de

que si no se han atendido ya se responderán está ya en ello pero le aseguro que también en el departamento hemos recibido muchísimas opiniones favorables

por parte de ertzainas que han expresado sin ningún tipo de remilgo

en cualquier caso efectivamente habrá tiempo para analizar el comportamiento de estos vehículos que cumplen con todas las prescripciones del pliego de condiciones con todas y cada una de ellas como no podría ser de otra manera

y como le digo habrá tiempo de estudiar estos vehículos incluidos los aspectos ergonómicos y desde luego

la tónica de este departamento y el criterio no es que nadie se fastidie a la hora de realizar su trabajo todo lo contrario trabajamos cada día para que

trabaje en las mejores condiciones eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

sí señora san josé a usted y a mí este parlamento nos va a odiar porque nos toca cerrar casi todos los plenos de control pero nos parecía importante hoy preguntarle por una cuestión que hemos conocido

inspección de trabajo ha obligado a e i te be a regularizar las condiciones de trabajo de sesenta y cinco trabajadoras y trabajadores al parecer

euros quisiéramos conocer su opinión como consejera de trabajo

sobre esta cuestión quisiéramos conocer su opinión sobre el hecho de que un ente de estas características un ente público sea sancionado por incumplimiento en normativa de respeto a los derechos de las y los trabajadores por parte de inspección de trabajo dependiente

eguerdi on guztioi señor hernández la actuación del sistema de inspección de trabajo y seguridad social en euskadi se acomoda desde el año dos mil doce a una nueva realidad institucional

a la comunidad autónoma del país vasco en materia de función pública inspectora de la inspección de trabajo y seguridad social

de modificación de medidas patrimoniales y personales adscritos a las funciones y servicios traspasados por la administración del estado a la comunidad autónoma del país vasco en materia de función pública inspectora

la transferencia realizada con efectos de uno de enero del dos mil doce implica la cotitularidad del servicio de inspección

por parte de la administración general del estado y de la comunidad autónoma del país vasco las actuaciones del sistema de inspección de trabajo y seguridad social a efectos de una adecuada planificación

materiales de intervención prevención de riesgos laborales relaciones laborales y empleo competencias de la comunidad autónoma de euskadi

por lo tanto todas las actuaciones llevadas a cabo en materia de seguridad social como es el caso que nos compete en esta pregunta

y no de la dependiente del departamento de trabajo y justicia

por lo que para obtener las explicaciones que solicita deberá dirigirse a las instancias oportunas eskerrik asko

sí señora san josé usted no me ha respondido

quién incoa el expediente y nos dice que le pidamos las explicaciones nosotros le hemos

y además en el decreto que regula la estructura de su departamento se dice que entre sus funciones está

de toda la inspección de trabajo y sería grave que nos diga que ustedes no hacen eso que no coordinan yo no creo que sea así porque hace dos semanas yo le vi a usted en rueda de prensa con el señor loza delegado de gobierno

los logros de inspección de trabajo en el país vasco diciendo que habían destapado más de siete mil contratos irregulares

no sé si entre esos estarían los de e i te be o no pero alguna coordinación debe haber y alguna información debe tener usted usted es la máxima responsable en nuestra comunidad autónoma de trabajo entonces nos cuesta creer que usted no tenga ninguna información

las infracciones de las que estamos hablando en nuestra opinión son graves son graves sobre todo porque estamos hablando de un ente público en nuestra opinión lo de hoy se suma

en e i te be que fue en nuestra opinión indecente se suma a sentencias una tras otra que han obligado a la contratación de más de un centenar de indefinidos no fijos que estaban

se suma a indemnizaciones y multas de miles de euros por fraude laboral y las denuncias hoy en día continúan y por lo tanto pensamos que las infracciones

dimita o para que esta cámara pida su cese nosotros pensamos que a una entidad pública se le debe exigir una actitud exquisita con el respeto a las normas en general

una vez más la política en materia laboral que lleva la e i te be nos preocupa porque no es la primera vez que se sanciona en materia de derechos laborales

nos preocupa que esto sea recurrente y por lo tanto nos preocupa y creemos que el departamento que usted dirige va a tener que estar muy encima de este ente público porque no puede ser que continuamente se ponga

en un ente que es público que está pagado con el dinero de todas y de todos y pensamos que usted debería tener más información al respecto y le pedimos desde luego que esté
encima de e i te be por los hechos que venimos conociendo eskerrik asko eskerrik asko

sobre un expediente que desconozco y no le puedo dar esa opinión sobre ese expediente las dos inspecciones

pero cada inspector y cada inspectora tiene una autonomía técnica y funcional en todas sus actuaciones y además tenemos que garantizarles en sus actuaciones desde luego cualquier influencia indebida sobre

sus expedientes efectivamente dimos una rueda conjunta con datos no sobre

profundizamos en ningún expediente dimos datos y además

coordinación y esa colaboración que incluye

no solamente a nivel de comunidad autónoma sino en coordinación con la administración del estado y llevar a cabo ese plan director por un trabajo digno ha conseguido que euskadi

contratos temporales y a tiempo parcial es necesaria esa coordinación y cooperación y desde luego vamos a seguir en esa línea eskerrik asko